en el pasado consejo de gobierno lo presentó en sus grandes trazos

ni original decir que la pandemia nos ha dejado muy tocados en todos los ámbitos desde el sanitario consecuencia principal hasta el económico y social provocando incrementos de paro y deterioro de los tejidos empresariales y de servicios por todo ello no solo entendemos oportuno el plan anunciado y esbozado por usted sino que estamos con el gobierno que usted preside en que este plan ha de ser la columna vertebral de su acción política en los próximos años

ante la crisis provocada por un hecho inesperado todo ha de reconducirse como nadie lo esperaba hace solo un año

para volver a la senda de una sociedad más justa equilibrada

por eso entendemos este plan a pesar de acusaciones de inactividad y parálisis a su gobierno fruto de dialécticas facilonas estériles y derivadas

como un motor enormemente positivo y esperanzador para la sociedad vasca independientemente del anuncio de la iniciativa y del esbozo del esqueleto del plan

quisiéramos conocer cuál es la previsión para su puesta en marcha eskerrik asko eskerrik asko tellería jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

euskal ekonomia birmoldatu berritu eta berrasmatu behar dugu este marco general incorpora un compromiso presupuestario del gobierno

en reactivación económica tres mil setecientos millónes en avales a empresas y personas autónomas

que ha supuesto un nuevo paso en el reconocimiento de la singularidad del autogobierno vasco en dos semanas contaremos también con las previsiones de recursos acordadas en el seno del consejo vasco de finanzas y sobre esta base sostenemos

presupuestarias inversiones y programas al contraste con todas las instituciones agentes económicos y sociales este contraste es necesario porque esta crisis se produce en el marco de tres transiciones de carácter global

energética y climática sanitaria y social nos corresponde compartir una estrategia global de país para avanzar en una euskadi digital

y una euskadi inclusiva esta estrategia necesita de todas las aportaciones iniciamos este proceso con las tres diputaciones forales y los ayuntamientos la representación de las empresas y los sindicatos cámaras de comercio consejo económico y social cooperativas sociedades anónimas laborales etcétera el gobierno acude a estos encuentros con la voluntad de escuchar recibir aportaciones

el retraso por ejemplo en las ayudas complementarias a los erte cierto

que necesitamos necesitamos para poder tramitar los complementos de los erte nuestro compromiso

y abonar el complemento de ciento cincuenta euros acordado en la mesa de diálogo social prorrogado ahora hasta el treinta y uno de enero

la cultura las ayudas a la cultura hemos comprometido dos coma cinco millónes de euros hemos recibido trescientos treinta solicitudes

además hemos convocado una línea de subvención con dos millónes para micropymes del sector cultural las setenta y siete solicitudes recibidas están en tramitación cita por ejemplo la educación y efectivamente cita o yo cito la contratación de profesores se han realizado ya más de tres mil trescientos contratos de sustitución

señora vicelehendakari estamos en un momento en que

económica y social de euskadi para que nadie quede atrás sin ánimo de entrar en una

hay algunas cuestiones que todos podemos tener claros antes de la pandemia creábamos empleo y los indicadores de actividad estaban en positivo la pandemia de la covid diecinueve y sus consecuencias sociales económicas han puesto al mundo y también a euskadi

salíamos de una crisis económica provocada por los sectores financieros y nuevamente nos toca enfrentarnos como sociedad a la que ahora se deriva de esta crisis inicialmente sanitaria

así como los complementos acordados a través del dialogo social impulsado por el gobierno vasco

cuyas prórrogas por cierto han sido esta misma semana acordadas han sido fundamentales en la defensa del empleo en lo peor de esta crisis pero es evidente que a pesar del éxito de este instrumento

no ha sido posible impedir la destrucción de empleo y con ello en euskadi después de unos años evolución positiva de las tasas de paro que eran inferiores al diez por ciento por primera vez desde la anterior crisis esa barrera se ha visto de nuevo sobrepasada señora vicelehendakari conoce usted muy bien y de primera mano el compromiso histórico de los socialistas con el empleo el nuevo gobierno vasco se ha fijado como objetivo volver a la senda del crecimiento del empleo y volver

la tasa del paro de hecho este es el primer eje de actuación en el acuerdo suscrito por el partido socialista y por el partido nacionalista vasco y podría decir muchas más cosas pero a nuestro juicio

junto a la reactivación de nuestra economía productiva debe ser

por eso señora vicelehendakari es por lo que le preguntamos cómo pretende abordar su departamento el reto de conseguir revertir la tendencia del desempleo gracias

en euskadi que buscan empleo y que no lo encuentran hay

menos que el mes pasado pero hay veintinueve mil doscientos once más desde febrero cuando estalló la pandemia y hay setenta y nueve mil veintisiete mujeres que siguen buscando empleo y es verdad

pero siguen siendo la mayoría en las listas del paro sobre todo las mayores de cuarenta y cinco años y todavía casi la mitad de los desempleados lo son de larga duración

ochenta y dos personas más en esta situación gobernuak

kemen handiagoa ematen digutela planteatu dugun proiekturako el gobierno no va a esconderse nunca ante esta realidad tan dura por la que están pasando miles de familias pero tampoco vamos a ocultar los datos que nos invitan a la esperanza

empleos en los peores momentos el ochenta y cuatro por ciento de esos trabajadores ya se han reincorporado a su puesto

que los refuerzan la extensión de los erte hasta el treinta y uno de enero en un acuerdo de la mesa de diálogo en madrid

fruto del diálogo social aquí en euskadi a mi departamento le corresponde ayudar a las empresas a resistir y prepararlas para competir necesitan trabajadores formados para la digitalización la transición ecológica la economía circular

de calidad los objetivos generales en cifras los ha explicado el lehendakari pero en ese programa y en la estrategia que lo debe desarrollar no solo queremos poner cifras queremos poner a las personas trabajadoras y a las empresas en el centro de nuestra actuación y lo vamos a hacer

y con igualdad innovación porque a un momento inédito necesita respuestas nuevas vamos a pegar los planes formativos a la realidad económica y revisaremos lo que haga falta para que lanbide sea útil para que las empresas encuentren a los trabajadores preparados para lo que realmente necesitan

porque necesitamos a los agentes sociales pero también al resto de instituciones cuanto más colaboremos mucho más eficaces seremos igualdad porque de esta tenemos que salir

descolgado especialmente a los colectivos con mayores dificultades tanto los jóvenes como los mayores de cuarenta y cinco años mujeres o personas con discapacidades y es un reto inmenso que exige un gran consenso de eso ha hablado con los agentes sociales con los que me reuní

y quiero también contar con este parlamento porque trasladaremos a la ciudadanía que somos capaces de sumar por encima de nuestras diferencias

trabajamos ya la estrategia de empleo contamos con los agentes sociales con los ayuntamientos las diputaciones y el gobierno de españa pero sobre todo tenemos

que siguen en paro y que nos necesitan a todos nosotros eskerrik asko

andrea como usted sabe perfectamente los puntos de atención continuada son unos

sistema de salud pública son importantes

la ciudadanía que pensamos que los agradece porque suponen un servicio fundamental fuera de los horarios de los centros de salud

pero también porque suponen una pieza clave fundamental dentro del propio sistema

evitan que las urgencias hospitalarias puedan estar sobrecargadas

estrés sanitario sufrir colapsos durante esta pandemia ustedes

han tenido que reorganizar muchas cosas somos conscientes

cambios en horarios recortes en horarios y han tenido una repercusión negativa para la salud pública y para el servicio que se da

estamos preocupados por la situación y por el futuro de los puntos de atención continuada

su opinión sobre la actual situación de los puntos de atención continuada sobre sus intenciones de cara al futuro y sobre todo cómo valora el número de puntos que existen y los recursos que tienen en especial los recursos humanos que tienen eskerrik asko

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok egun on guztioi la principal función del punto de atención continuada efectivamente
es cubrir los tramos horarios en los que los centros de salud cierran ciertamente como bien apuntaba usted la pandemia del covid diecinueve ha obligado a reorganizar en función de cada coyuntura

el funcionamiento de la práctica totalidad de los servicios sanitarios también de los pac en euskadi y en todos los países del mundo pero todo ello sin menoscabo de la atención que se presta de hecho actualmente hay más

en el conjunto de euskadi habiéndose producido un aumento del personal que los atiende el hecho de que el volumen de asistencias a urgencias no se haya incrementado viene a avalar la suficiencia de la prestación ofrecida por los pac beraz zure galderari erantzunez

la respuesta aunque la verdad es que no nos quedamos tranquilos sabiendo que ustedes consideran que la situación de los puntos de atención continuada es buena porque en nuestro grupo pensamos

porque se han cerrado diferentes puntos de atención continuada es verdad que ustedes dicen que de manera coyuntural pero la verdad es que también hemos visto

en gasteiz se cerraron el gobierno vasco en aquel momento también aseguró a los médicos que se iba a volver a abrir el pasado cinco de octubre finalmente se cerró de manera definitiva con lo que eso

y pensamos que eso obliga a mucha gente a desviarse a las urgencias hospitalarias

y estamos preocupados por el futuro de estos puntos

y en concreto para los puntos de atención continuada y por lo tanto nosotros

destinen los recursos necesarios tengo que serle sincero yo esperaba otro tipo de respuesta yo lamento que ustedes estén satisfechos con la actual situación de estos puntos nosotros pensamos

que ha dejado de acudir al sistema público de salud cuando hubiera tenido necesidad de acudir

no se ajustan a la realidad cuando dice que no han aumentado las urgencias hospitalarias nosotros pensamos que estos puntos son fundamentales antiguos responsables de los pac han dicho en más de una ocasión que los pac podían atender con mayor agilidad el veinticinco por ciento

que hay que dotarlos de más medios y esta es alguna de las cosas que creemos que les están pidiendo los profesionales de la salud que como usted sabe estos días se movilizan entonces lo que nosotros les pedimos

que se sienten con ellos a hablar de estas cuestiones y les pedimos que reconsideren esa valoración positiva que hacen ustedes de la actual situación de los puntos de atención continuada porque sabemos que en muchos sitios y la gente nos lo traslada tienen auténticos problemas problemas para desplazamiento

insisto la actual situación de los pac responde a una a la coyuntura y a la demanda asistencial presente en la medida en que gestionamos un servicio público debemos ajustar los recursos que prestamos a la demanda

a las y a los profesionales que priorizaran sus vacaciones en el periodo de verano con la previsión de una posible mayor incidencia del covid en los próximos meses

reincorporado los recursos de cualquier sistema público son limitados y hay que gestionarlos de modo eficiente eso es lo que pretendemos la solución no siempre es más y más sino gestión responsable y eficaz y esto no vale solo para los pac

no cabe hablar de no contrataciones de recortes cuando son los propios datos quienes avalan por sí solos y con contundencia son miles

en estos momentos por encima de la plantilla habitual y sí

lo que dije desde que accedí a esta responsabilidad

y así sigue porque creo que es el diálogo y no la confrontación sistemática la vía

en qué plazo espera usted lehendakari solucionar las graves deficiencias

esenciales dependientes del gobierno vasco eskerrik asko iturgaiz jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

señor lehendakari le hemos pedido un plazo me imagino que nos dará un plazo por el bien de la sociedad vasca

el diagnóstico de la sociedad lo hacen cada día las decenas de miles y miles de vascos

o por teléfono a diferentes instituciones que conocemos muy bien en nuestra tierra como es

y le puedo asegurar que esa gestión la ciudadanía la está suspendiendo

son situaciones de mal funcionamiento de dilaciones que causan

a miles y miles de vascos mire usted yo le voy a poner de esta misma semana de finales de septiembre dos ejemplos

una persona diecisiete llamadas en bizkaia a un centro de salud para conseguir hablar con alguien

y una semana más para la cita o de lanbide otra persona se lo dije ya y lo recordará en el debate de investidura que todos sabemos que es un desastre pero era un desastre desde antes de la pandemia es verdad que ahora es más fácil contactar en marzo o en abril con lanbide

hay miles de expedientes todavía sin resolver que debieron ser resueltos hace meses como los complementos los dos ejemplos son reales y son tan reales de esta misma semana afectando

por eso yo quiero decirle que yo sé que hay otros servicios de administraciones que tampoco están funcionando como el inss el instituto nacional de la seguridad social que competen a gobiernos que por cierto

o en diputaciones o en ayuntamientos hay también otras instituciones

qué va a hacer usted señor lehendakari cuándo funcionará con agilidad

cuándo será posible relacionarse con lanbide por estos medios con total normalidad o lo que es lo mismo está usted dispuesto a comprometer un plazo ante esta cámara o sea ante los ciudadanos vascos para poner remedio

la saturación los retrasos infinitos en la relación no presencial con la administración y también le quiero preguntar qué medios pondrá para lograrlo

que no esperan que no pueden esperar a un nuevo presupuesto sino tenemos que saber

a todo esto que le estoy preguntando porque esa es su responsabilidad no limitarse a ver lo mal que lo hacen otros sino hacerlo mejor de lo que usted mismo y su gobierno lo han hecho

eta onartu dugu onartu dugu eta onartzen dut no hemos ocultado los problemas en la prestación de los servicios públicos los primeros meses sufrimos la saturación

o las solicitudes de información en zuzenean lo reconocemos lo reconozco y hemos ido mejorando y la atención usted me pide plazos de solución y yo me refiero más con hechos porque más que plazos la cuestión es la mejora continua día a día no poner plazo sino mejorar día a día y en este sentido hechos pues se han duplicado las consultas telemáticas a zuzenean

todas las ayudas de pago único de los servicios sociales han sido contratadas cien personas más en lanbide para tramitar los expedientes todas las solicitudes de ayudas

los servicios jurídicos en materia de extranjería mediación familiar o berdindu funcionan con normalidad también el teléfono del consejo sanitario

en respuesta a las necesidades de la pandemia en esta situación tan compleja

de lo que es la mejora continua en todo caso reconozco los problemas y vamos a seguir trabajando en la mejora continua de los servicios públicos priorizando los esenciales de salud educación y protección social no he negado las dificultades señor iturgaiz y no creo que me haya escuchado a mí hablar de lo mal que puedan estar haciendo otros nunca

seamos honestos esta es una realidad desconocida y para la que nadie

es cierto que se han cerrado de forma puntual algunas oficinas de atención afectadas por el coronavirus

también es cierto que se han adoptado y reforzado las medidas de protección para trabajadores y usuarios en los espacios de atención ciudadana lo que ha permitido

reducir los plazos de citación a una media de tres días esta situación ha venido para quedarse y nuestro objetivo es que la relación entre administración y ciudadanía pueda gestionarse también de manera telemática la pandemia va a ser el mayor motivador para afianzar la digitalización de la administración pública

la caída del pib los erte el desempleo comercios cerrados

la falta de perspectiva laboral para nuestros jóvenes uno de los elementos más significativos que se pueden otorgar desde la política como garantía de lucha eficiente contra esta crisis es la estabilidad institucional las instituciones tienen la obligación de trasladar las certidumbres a los mercados y a toda la sociedad española

cree usted que el cuestionamiento de las instituciones favorece la inversión y el desarrollo económico de nuestra comunidad autónoma muchas gracias

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez dice usted que las instituciones tienen la obligación de trasladar las certidumbres necesarias

pregunta formulada plantea a los inversores y ofrecer seguridad jurídica a las personas que aportan sus recursos económicos para llevar a cabo iniciativas que generen empleo lo comparto plenamente y estos ocho años hemos apostado y logrado la estabilidad institucional en euskadi no solo en el gobierno vasco también en las diputaciones forales y en los ayuntamientos

usted es cómplice necesario del desprestigio que sufren las instituciones en españa lo ha dejado claro al manifestarse en contra del tribunal constitucional por la inhabilitación de quim torra

hay una desproporción evidente entre mantener una pancarta reivindicativa no atentatoria contra derecho humano alguno

algún ingenuo podrá decir que los derechos que vulnera quim torra no tienen ninguna importancia únicamente atenta contra la transparencia

minucias minucias que a ojos de la multinacionales de las que tanto depende nuestra economía son casos de falta de rigor

y usted señor lehendakari también cuestionó la intensidad de la pena como si gozase de una aureola de legitimidad que le sitúa por encima de las más altas instituciones del estado

psoe y podemos que por sus actuaciones a los hechos me remito lejos de dotar de estabilidad a las instituciones buscan destruir los pilares fundamentales de nuestra nación la justicia y la monarquía hemos visto sus declaraciones irresponsables respecto a la justicia de nuestro país

del vicepresidente segundo pablo iglesias y el ministro de consumo alberto garzón incluso hemos visto desde la presidencia del gobierno

acudir a la entrega de despachos a la nueva promoción de la escuela judicial con sede en barcelona es el argumento de la convivencia motivo suficiente

en vox tenemos claro que la convivencia no es la razón es solo una excusa

no le hemos visto señor urkullu condenar estos ataques desafortunados a la corona

han expresado su preocupación respecto a los ataques a la corona por la innegable falta de estabilidad que generan todo lo contrario de lo que necesita nuestra maltrecha economía y para terminar fomenta la estabilidad mantener un gobierno el de pedro sánchez que pacta con bildu con nocturnidad y alevosía la modificación de la reforma laboral

en conclusión el covid diecinueve ha dinamitado cualquier atisbo de estabilidad y certidumbre en nuestra sociedad

soy responsable me hago responsable y me ratifico en todo lo dicho mire centrémonos en euskadi euskadi es hoy garantía de estabilidad institucional lo ha puesto de manifiesto por ejemplo el éxito de las dos emisiones de bonos sostenibles de euskadi en el mercado financiando internacional y la acreditación por ejemplo también

le recuerdo que en febrero de este año mismo y leo literalmente el posiciona a euskadi como la mejor región de tamaño medio para invertir la pregunta que realiza señora martínez la debería responder usted misma porque su partido cuestiona permanentemente las instituciones democráticas del autogobierno vasco las herramientas jurídicas institucionales y políticas con que contamos y que son en realidad las que están favoreciendo tanto la inversión como el desarrollo económico

ustedes señora martínez no ocultan su añoranza de sistemas predemocráticos no creen en el autogobierno vasco ni mucho menos en nuestras instituciones singulares

el concierto económico la ertzaintza o el modelo vasco de protección social

se ha referido a la política del estado español no a la política vasca ni a las instituciones vascas

lo que ustedes en realidad persiguen que no es otra cosa que la inestabilidad institucional todo es mejorable sin duda pero la mejor prueba de que las instituciones funcionan

y defienden aquí sus postulados cuando en realidad son contrarios a este parlamento y les importa nada este parlamento y lo que representa considero sin embargo que su presencia y actuación en este parlamento va a tener el efecto contrario al que ustedes pretenden va a ayudar a poner en valor las instituciones propias

a que nos empeñemos más en reforzar nuestro autogobierno nuestra cultura nuestro idioma nuestros servicios públicos y nos va a impulsar a perseverar en lo que siempre hemos hecho mejorar las condiciones de vida y bienestar de todas las personas que vivimos en euskadi

en euskadi ha citado usted la monarquía y no voy a eludir la referencia señora martínez solo le pido que revise lo dicho por mí

el cinco de septiembre con motivo de mi juramente como lehendakari

el cinco de septiembre a partir de ahí le sugiero que analice también la oportunidad de republicanizar la monarquía que he planteado también

apertura modernización y legitimación social de la propia institución eskerrik asko eskerrik asko

se mide la evolución del país por los triunfos de la selección decir que emakunde desciende a segunda se entiende a la primera en un nuevo gobierno vasco

trasversal a todas las consejerías a pertenecer a una consejería nueva

un tanto frankenstein donde con la palabra igualdad

compartirá con justicia y políticas sociales un variopinto conglomerado y prosigue cuando en mil novecientos ochenta y ocho se creó emakunde nuestra situación era peor que la actual evolucionamos

treinta mujeres asesinadas por sus parejas o ex aunque otros hablan de sesenta y seis en euskadi hasta julio se habían registrado doscientos diez ataques contra la libertad sexual el paro

y al repasar las listas de parados convendríamos mejor decir paradas porque en todos los tramos de edad ellas son tristemente líderes es cierto en estos treinta años las mujeres en cargos directivos han pasado del nueve por ciento al treinta por ciento

también es cierta la mayor implicación de hombres en las actividades domésticas

el cuidado doméstico se sigue conjugando en femenino y finaliza informan ahora de que no cambiará la autonomía de emakunde

lo seguirá presidiendo si fuera así todavía resulta más innecesario y difícil de entender el para qué de este cambio con descenso a segunda

dicen que es una vuelta al asistencialismo de hace más de cuarenta años y reclaman diálogo la política de igualdad debe reflejarse en hechos

de confianza según ellas pedís votos de confianza pero no

denomináis a las personas que están saliendo públicamente de prejuiciosas aquellas que llevan años de trabajo institucional y académico militante y profesional

estructural que afecta a todos los ámbitos de la sociedad y en consecuencia la perspectiva de género ha de estar presente en todas las políticas y decisiones

al abordar otras desigualdades esta es una máxima que han seguido hasta ahora las políticas de igualdad en euskadi y que vamos a mantener y reforzar las políticas de igualdad de mujeres y hombres son políticas transversales

no hablamos de un colectivo sino de más de la mitad de la población en realidad de toda ella porque estas políticas inciden en toda la sociedad

dando un nuevo impulso a la transversalidad en todo el gobierno es al mismo tiempo favorecer

a todas las desigualdades directamente relacionadas con los derechos humanos un nuevo impulso al avance hacia una sociedad más igualitaria y justa que ponga la vida en el centro y en la que todas las personas tengan las mismas oportunidades para desarrollar sus proyectos de vida poner la vida en el centro

y de las mujeres en particular implica entre otros aspectos uno luchar contra todas las formas de discriminación reducir hasta eliminar la brecha salarial extender la protección social en tiempos de crisis dos impulsar las políticas de conciliación corresponsable de la vida personal

tres integrar en todos estos aspectos la perspectiva de género el objetivo del nuevo departamento de igualdad es reforzar las políticas de igualdad

favoreciendo la coordinación de todas las políticas e impulsando la transversalidad en todas las acciones de gobierno

el objetivo es potenciar un enfoque transversal de derechos humanos e igualdad en todas las políticas públicas poniendo en primera línea la igualdad de mujeres y promoviendo una política específica desde un organismo autónomo referente transversal en esta materia y cuyo órgano de gobierno preside el lehendakari

por primera vez se coloca la igualdad en el centro de la acción de un departamento que integra equipos con competencias y trayectoria en derechos humanos

cuidados diversidad políticas sociales y lucha contra la violencia contra las mujeres configuramos un nuevo departamento con competencias en materia de igualdad

el objetivo es sumar para fortalecer las políticas de igualdad de mujeres y hombres

autonomía de emakunde la presidencia de su órgano de gobierno por el lehendakari como presido otros consejos como presido otros consejos consejos que se celebran en lehendakaritza emakunde mantiene su sede estructura

se trata de impulsar medidas para fortalecer su acción como referente en materia de igualdad para el conjunto del gobierno y las instituciones vascas y esta decisión

incardinación de emakunde en toda una concepción de igualdad en toda una concepción de igualdad esta es la pretensión de la incorporación de emakunde

con mayúsculas se apuesta por la coordinación y la transversalidad de las políticas de igualdad en el seno del gobierno y en la relación con las instituciones y los agentes sociales así emakunde mantiene su participación

en la comisión interdepartamental para la igualdad en la comisión asesora

begira en la comisión de seguimiento del acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas del maltrato doméstico y agresiones sexuales

con la creación del departamento de igualdad justicia y políticas sociales damos cumplimiento a su objetivo estratégico

velar por que la responsabilidad de las cuestiones relacionadas con el adelanto de la mujer recaigan en las esferas más altas del gobierno que sea posible

en muchos casos dice esta tarea podría estar a cargo de un ministerio del gabinete

esta es la realidad ahora en el gobierno vasco por el contrario llama la atención

fue adscrito al departamento de relaciones ciudadanas e institucionales cuando en el año dos mil quince

allí ni presidencia ni departamento de igualdad pero no se escucharon voces críticas en todo caso reitero el firme compromiso de todo el gobierno con la igualdad

y todo el gobierno porque sin duda ha sido y va a seguir siendo una prioridad para toda la sociedad vasca a la que pretende representar este gobierno

que no hay que devolver o mejor dicho que se pagarán solidariamente entre todas las personas de europa durante treinta años

a destinar a proyectos y programas concretos en principio sin cuantías fijas por territorio

aurrean gaude agian ongi erabiltzen bada un elemento nuevo este sí no el enésimo refrito que se presentó el martes a nuestro entender buscando titulares donde no hay más que un peinado de presupuestos

ehunean es decir nuestros posibles proyectos seran cribados por madrid y después serán cribados por europa hori dudarik gabe

porque es muy tentador gestionar estos fondos como si fueran una bolsa de caramelos eta hemen bi bide daude bakoitza bere aldetik ibiltzea

manó una relación inicial una inicial de proyectos a financiar

con quién abierta a quién y además se supone que se iba a hacer pública el veinticinco de agosto no se ha hecho pública eso se dijo

en este parlamento y claro cuando hemos visto el listado hemos entendido

durante estos casi dos meses y por qué tantos sectores nos han venido a pedir que averigüemos a ver qué está pasando después hablaré más de ello pero déjeme adelantar que el listado que se ha mandado es por decir algo es de no creer aparte de ser una birria físicamente

por cosas importantes por la falta de perspectiva estratégica por la falta de perspectiva de país por la nula perspectiva de cohesión y por las ausencias inexplicables de amplísimos sectores sector académico diferentes sectores industriales etcétera gure ustez asko asko gehiegi dago jokoan

kudeaketa gobernuaren eskuan dago antes de responder a su interpelación permítame señor otero aclarar que el marco financiero plurianual no se denomina

sé que lo sabe ya que es el presupuesto para los próximos siete años en la actualidad está en vigor el correspondiente al periodo de dos mil catorce dos mil veinte y en julio de este año se presentó el avance de los

adicionalmente con motivo de la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas la unión europea lanza la iniciativa next generation con un presupuesto adicional

millónes de euros centrándonos en next generation quiero destacar

al tratarse de la primera vez que se plantea una forma de generación consistente en la mutualización de la deuda entre los estados de la unión impensable hasta hace bien poco algunos venimos reclamando

que europa debe ser valiente y parte activa de la solución de las crisis económicas globales no lo hizo en la crisis del año dos mil ocho ahora parece que quieren cambiar el rumbo

debemos no obstante ser prudentes porque el proceso es muy incipiente aún esperemos que se vaya concretando y consolidando

y mucho el impacto económico y social de la crisis sanitaria en tanto en cuanto las medidas de confinamiento

han incidido de forma desigual conscientes de esta situación el gobierno vasco trasladó

que se denominaba visión vasca para un plan de recuperación de la unión europea manifestando la necesidad de una respuesta europea mediante un plan de recuperación que permitiese hacer frente a la fuerte contracción de la economía europea en su conjunto

del mercado interior la gravedad del momento exigía una respuesta ambiciosa por parte de la unión europea y de sus miembros entendiendo que se enfrentaba al reto más importante desde su fundación

que tuviese en cuenta el interés común europeo que se materializó meses más tarde con el anuncio de la iniciativa

al plan marshall y que busca prestar apoyo financiero a gran escala para aplicar a las reformas e inversiones en los estados miembros

se desembolsarán en transferencias a los estados y

millónes en prestamos a través de siete programas distintos que serán

en este marco el marco de la recuperación y resilencia constituye en palabras de la presidenta

y se concibe como la herramienta fundamental para convertir los retos inmediatos que plantea la pandemia del coronavirus en una oportunidad

sino también para un crecimiento sostenible e integrador a largo plazo que suponga un cambio profundo nos encontramos ante una oportunidad histórica o al menos queremos que así lo sea

los beneficios colectivos que representa una financiación basada en la deuda mutualizada como para abordar con determinación las transformaciones necesarias que nuestro país debe emprender para garantizar la sostenibilidad futura de su tejido

todo ello buscando respuestas locales a retos que son globales y que por lo tanto pueden replicarse en otros lugares si somos capaces de transformar esta crisis

empezando este gobierno y por este parlamento estemos a la altura de este momento con respecto a lo que estamos haciendo en este contexto de momento

interdepartamentales e interinstitucionales así como público privados que puedan encajar en el marco establecido en el mecanismo

y recuperación la falta de muchas respuestas que se deben dar en el estado sobre la gestión de los fondos y el papel de las comunidades en esta gestión no nos ha impedido avanzar en la concreción de actuaciones susceptibles de conformar

por nuestra parte aspiramos a que nuestros presupuestos del veintiuno terminen recogiendo el importe que nos corresponda con un claro criterio de adicionalidad desde el gobierno vasco estableceremos tal y como anunció el miércoles el lehendakari una organización

y flexible de dar respuesta al ingente reto multinivel y que tenga en cuenta a todas las administraciones públicas y a los agentes y actores socioeconómicos el reciente decreto de áreas del lehendakari era consciente de la necesidad de una cierta organización específica cuando

de economía y hacienda con el contenido de seguir y gestionar la política de cohesión europea planificación y análisis de los fondos europeos de recuperación y resilencia nuestra intención en definitiva es poder enviar al gobierno españa

lo antes posible para que se tengan en cuenta en los plazos apropiados

proiektuak aurkezteko eta ekarpenak egiteko ez dago markorik y usted me dice el proyecto es incipiente no sé cuánto de incipiente es en abril el veintiuno ya se decía el setenta por ciento

así que no sé si estamos en un proceso tan incipiente y de hecho no estamos en un proceso tan incipiente porque entre otras cosas la unión europea en el después del acuerdo del consejo sacó una comunicación en la que hablaba de que

a abrir un amplio diálogo político que dé cabida a todas las partes interesadas dónde está abierto ese marco de diálogo político orain arte beste gauza bat egin da

y ustedes me corregirán si no estoy en lo cierto se le encargó a price waterhouse cooper al de asier atutxa que preparara a todo correr

el doce de agosto ustedes me dirán si esto no es verdad diputazioak kontutan hartu gabe

abiadura handiko trena gehi iberdrola gehi petronorren proiektutarako doaz o sea herramientas nuevas pero el estilo suena a bastante viejo bastante viejo y hay cosas que llaman muchísimo la atención el famoso proyecto de hidrógeno de petronor

una con sesenta y siete millónes y otra con setenta y seis millónes de inversión en total ciento cuarenta y tres cuánto se asigna

pero no sé si esto tiene mucho sentido no gehiago

iba a hablar de la pasión según san juan pero voy a hablar de la transición ecológica según el pnv

lo que entra dentro del capítulo de transición ecológica para el pnv según estos planes presentados guggenheim urdaibai ciento cuarenta millónes supersur ciento ochenta y siete

varios de suelo industrial ochocientos cincuenta zabalgarri veinticinco

millónes de euros sería un buen epitafio para este gobierno

y después gloria o sea la lista de verdad la lista de verdad vale que es un borrador vale que se pueden hacer aportaciones vale que cambiará pero

de un de un sueño desarrollista de otra época

y ya hay más proyectos sobre la mesa lo que no sabemos es dónde está la mesa sobre qué mesa están esos proyectos hay otra cosa

somos unos quejicas impenitentes de todo lo que hace el gobierno lo digo también por el resto

todos están en bizkaia nosotros veníamos aquí a hablar de que hay que superar la perspectiva

pero es que ustedes lo han superado pero por otro lado no nos encontramos

que no be de bascos sino del partido nacionalista de bizkaia y me explico

este pequeño cuadro resumen de los dónde están los liderazgos de estos proyectos esto es lo que lidera el gobierno vasco número de proyectos esto la diputación de bizkaia el estado europa iberdrola gipuzkoa y araba suso

araba cero proyectos lidera en todo este plan

para hablar de equilibrio territorial pues esto es lo que tenemos esta es la distribución de los de los planes tractor no sé si es para que en madrid los defienda aitor

eta diru asko dago bitartean como le decía los pasos que estamos dando para elaborar euskadi net veinte veintiséis son en primer lugar la definición del planteamiento estratégico y marco conceptual a cargo del departamento de economía y hacienda se trata de recoger de forma

que se programen hasta el año veintitrés y se ejecuten hasta el veintiséis

en su apuesta por la recuperación en términos de temáticas contenidos plazos

segundo la recogida de información de los proyectos a partir de la guía presentada por la comisión el pasado diecisiete de septiembre

viables que estén alineados con los ámbitos marcados por europa que dispongan de los recursos suficientes para su lanzamiento y sean sostenibles a futuro factibles técnicamente

y medibles con indicadores de impacto también

idoneidad de los proyectos presentados y la decisión definitiva de los proyectos a incorporar en el plan que corresponde al consejo de gobierno

los departamentos inversores el departamento de economía y hacienda y la propia lehendakaritza

que son promover la cohesión económica y social en el territorio de la unión europea fortalecer

buscando una capacidad de respuesta ágil que sea justa sostenible e inclusiva y que reduzca la vulnerabilidad de los sistemas de salud y que garantice las cadenas de suministro críticas mitigar el impacto económico y social de la crisis buscando

de la respuesta en su conjunto apoyar las transiciones verde un treinta y siete por ciento del plan deber ir destinado a este objetivo

y mostrar la coherencia con los planteamientos europeos recogidos

así como los planteamientos estatales recogidos en sus respectivos planes nacionales de energía y clima como usted sabe también hay diez palancas o temáticas a las que hay que tener en cuenta y que son

el aumento de la movilidad eléctrica la rehabilitación y eficiencia energética

de los servicios en la nube big data aumento de las competencias digitales refuerzo de la ciencia y el sistema sanitario reciclaje de parados y trabajadores

mientras que la información procedente de la unión europea nos habla de siete ámbitos emblemáticos que guardan bastante relación con las diez palancas que le acabo de señalar

complejo y de momento con pocas certezas lo que sin embargo no nos impide

sin pausa de hecho estamos ya trabajando con ambición además con ambición de país no lo dude

de los programas operativos del feder y del fondo social de empleo con los aparentemente

también la emisión durante los tres últimos años de los bonos sostenibles en el marco de la política de endeudamiento y que nos

así como el desarrollo ágil de las inversiones financieramente sostenibles que hemos tenido la oportunidad de desarrollar como consecuencia de los superávit de las cuentas públicas de los años

insisto que desde el gobierno afrontamos con mucha responsabilidad e insisto también con espíritu colaborativo y por supuesto como antes le decía sería muy importante contar con su valiosísima colaboración así como

ha estado ocupando el puesto de consejera de educación del gobierno vasco durante ocho años ocho años en los que hemos encontrado

denuncias de asociaciones de niños con necesidades especiales improvisación bandazos y promesas incumplidas

a un número de aulas cerradas a fecha de hoy muy mucho más alto que la media nacional además de un nivel de calidad de la enseñanza

con peor comprensión lectora que el resto de españa etcétera etcétera

creo que con estas credenciales podemos

ha sido deficitario en términos educativos diríamos que merece un claro suspenso y suponemos que el gobierno y el lehendakari comparten este punto de vista porque no ha contado con ella para

su nueva etapa de gobierno sin embargo nos encontramos con la sorpresa de que es compensada

de viceconsejera ante lo cual nos preguntamos

cuál es el proceso cuáles son los criterios por los que el lehendakari

es la persona más adecuada posible para ocupar este puesto eskerrik asko gil jauna erantzuteko lehendakaria zurea da hitza

no voy a entrar en lo que son consideraciones o evaluaciones que se pueden hacer a lo que ha sido un tiempo de ocho años

porque en ese sentido me remitiré a lo que el propio informe del consejo escolar de euskadi

emitió y me voy a centrar en la cuestión que usted ha planteado en su pregunta y

y la innovación son razones de confianza de mérito y de capacidad eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

mérito y capacidad confianza que es algo así como decir porque podemos y queremos

demostradas en la ejecución durante estos años el problema es que ese tipo de decisiones no ayudan para recuperar la confianza que la ciudadanía tiene

de que entre pocos se reparten los puestos de que da igual las apariencias y que se hacen estas cosas sin sonrojarse al final la conclusión que saco de su respuesta es que no hay criterios

claro por el cual quizá encontrásemos otras personas más capaces señor lehendakari yo creo que estas cosas por el bien de todos hay que explicarlas muy bien creo que es bueno para todos también para el gobierno vasco para las instituciones
y también para los ciudadanos gracias eskerrik asko gil jauna

plantea usted la necesidad de criterios y una explicación clara espero poder explicarme suficientemente y de manera convincente razones de confianza

de diciembre del año dos mil doce y ha tenido ocasión de comprobar su capacidad de trabajo

la dedicación y la responsabilidad compartida ha generado un elevado grado de confianza en su trabajo y su persona y pienso que la confianza es una razón fundamental para formar

ha formado parte del consejo vasco de ciencia tecnología e innovación

doctora en ciencias químicas acreditada como catedrática vicerrectora del campus de gipuzkoa de la universidad del país vasco miembro del consejo rector de biodonostia entre otras

capacidad para dirigir la política científica de este país y la investigación básica universitaria para impulsar la estrategia universidad más empresa y desarrollar el plan estratégico del sistema universitario vasco

en su mandato capacidad para coordinar y dirigir los centros de excelencia investigadora de euskadi

y orientar los grupos de investigación universitaria en la estrategia de especialización inteligente ris tres euskadi capacidad para dinamizar la captación de talento

internacional al frente de ikerbasque responsabilidad que le cupo a ella para impulsar la estrategia steam especialmente en el ámbito de las mujeres jóvenes

a lo que usted ha dicho también con la consideración sobre el relevo

cada etapa exige adecuar las personas de un equipo a unas circunstancias cambiantes

en circunstancias muy difíciles y yo así lo reconozco y valoro

es una prioridad y hemos comprometido una inversión creciente con un incremento anual del seis por ciento en los presupuestos públicos

y desarrollar las funciones que le corresponden como comisionada para la ciencia la tecnología y la innovación en razón de capacidad en razón de mérito

buenos días a todos hoy vengo a trasladar aquí una preocupación que muchas familias vascas me han hecho llegar

tenían el objetivo de hacer un homenaje a un terrorista que se había suicidado días atrás

para vox estas acciones implican tres consecuencias dramáticas que nos preocupan supone un peligro para las nuevas generaciones que se eleve a terroristas a la categoría de héroes

se justifica un relato falso ya que nunca existieron dos bandos eta asesinaba secuestraba y extorsionaba y el resto de ciudadanos españoles sufríamos las consecuencias

actos de ensalzamiento al terrorismo en su conjunto catorce homenajes a miembros de eta tres jornadas de lucha

setenta y tres pintadas y pancartas cincuenta y siete manifestaciones a favor de que asesinos de ciudadanos

secuestradores y atracadores varios fueran amnistiados por haber pertenecido a eta dieciocho actos de distinta naturaleza en dos mil diecinueve fueron ciento diez

pero un total de ciento sesenta y seis tuvieron lugar en este año

han humillado a las víctimas y han seguido sembrando el odio intentando justificar la violencia ejercida por eta a lo largo de cincuenta años les pondré algunos ejemplos

recibimiento a marta igarriz más de un centenar de personas

los asistentes al recibimiento le hicieron un pasillo de honor que igarriz atravesó mientras era aplaudida y vitoreada

varias localidades de gipuzkoa celebran el día del gudari eguna

la fecha elegida el aniversario del fusilamiento de dos etarras juan paredes y angel otaegi podemos seguir veintinueve de septiembre de dos mil veinte beasain gipuzkoa

aparecen pintadas en un local de beasain al que suele acudir un agente de la ertzaintza en la pintada aparece el nombre del agente junto a la palabra zipayo nombre con el que eta comenzó a calificar despectivamente a la ertzaintza a mediados de los años ochenta

recibimiento a oihane bakedano centenares de personas niños incluidos

se le hizo un pasillo de honor que atravesó mientras recibía aplausos de los asistentes

más de un centenar de personas reciben en bilbao a este etarra el recibimiento contó con fuegos artificiales dedicados al terrorista y los asistentes le dedicaron un homenaje haciéndole un pasillo de honor y aplaudiendo a su paso catorce

manifestación a favor de la amnistía para los presos etarras a raíz de la huelga de hambre iniciada por el etarra iñaki bilbao una decena de personas se manifiestan en bilbao

alsasua navarra pancartas con el rostro de igor gonzález y de petición de amnistía para los presos de eta

y por último solo he mostrado las últimas acciones que se han celebrado en este último trimestre el homenaje a los terroristas celebrado el día doce de septiembre en la plaza moyúa de bilbao hay una concentración en memoria de etarras fallecidos un centenar de personas se congregan frente a la delegación del gobierno en bilbao

sobre la fachada de la delegación se proyectan consignas de la izquierda abertzale mientras se iba recordando a diferentes etarras fallecidos con aplausos de los asistentes el acto organizado por sortu y al que asistió su líder arkaitz rodriguez

uno de los últimos jefes de eta por todo ello y con el máximo respeto tengo a bien realizar esta interpelación al vicepresidente primero y consejero de seguridad josu erkoreka cuáles son los propósitos de su gobierno en relación a la celebración de homenajes a miembros de la banda terrorista eta que han generado el terror a lo largo de toda la geografía española asesinando
y extorsionando muchas gracias eskerrik asko martínez andrea erantzuteko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez como probablemente podrá usted imaginar la cuestión que usted plantea

en este momento no es en absoluto inédita en esta cámara ha sido planteada en numerosas ocasiones con anterioridad

prácticamente en todos los formatos en los que es posible presentar una iniciativa

oral como proposición no de ley incluso como interpelación por no ser seguramente no es ni una cuestión que habiendo sido debatida con frecuencia en el pretérito remoto no lo haya sido en los últimos tiempos porque

los diarios de sesiones de las postrimerías de la pasada legislatura podrá comprobar

en que se mantuvo aquí mismo en el pleno un debate importante sobre esta misma cuestión en torno a una proposición no de ley planteada por un grupo parlamentario que desembocó

todos los grupos votaron a favor excepto uno que tampoco votó en contra sino que se abstuvo hubo reproches cruzados hubo opiniones encontradas

y lo ha sido todavía en tiempos muy recientes en las postrimerías de la última legislatura le recuerdo que estamos en los albores

y precisamente porque es una cuestión que ha sido bastante debatida en la cámara tengo para mí que las posiciones de los diferentes grupos parlamentarios están bastante decantadas en torno a la cuestión

legítimamente cambiar de criterio la posición del propio gobierno en esta materia

no pueda diferir en exceso de la que hace exactamente un año ofreció la consejera que me precedió en la responsabilidad del departamento de seguridad a una pregunta muy similar prácticamente idéntica a la que usted plantea hoy decía la señora

insisto un año el tres de octubre del año dos mil diecinueve

este es el criterio que ha seguido la actuación del departamento de seguridad en la pasada legislatura y es

legislatura que acabamos de comenzar es no puede ser de otra manera el criterio que va a guiar la actuación de este departamento en la legislatura que comienza y se preguntará y cuál es

de los pronunciamientos de los jueces y tribunales que tienen ocasión de emitir resoluciones en relación con este asunto en los últimos tiempos

y de desarrollos completamente distintos usted ha hecho una enumeración

su desarrollo es completamente distinto y tienen naturalezas enormemente heterogéneas

en el derecho de reunión en el ámbito del derecho de reunión un derecho constitucional

y ambos dos derechos fundamentales recogidos no en cualquier parte de la constitución sino

la sección primera del capítulo segundo del título primero que recoge los

de protección por parte del propio texto constitucional y no puede ser otra manera porque tal y como están recogidos esos derechos en el texto constitucional es una redacción es una concepción que prácticamente se reproduce

y en las declaraciones internacionales de todos los organismos que han hecho proclamaciones o tienen aprobados documentos oficiales vinculados a derechos fundamentales y libertades públicas

recogidos en los artículos veinte y veintiuno de la constitución el veintiuno el derecho de reunión y en el veinte

están estrechamente entrelazados entre sí lo dice el tribunal de europeo de derechos humanos y lo dice también el tribunal constitucional

dice la constitución en este punto que el ejercicio de este derecho no requerirá autorización previa

o manifestaciones que tengan lugar en lugares de concurrencia pública

comunicación a la autoridad gobernativa que no podrá prohibirlos más que

o cuando existan razones fundadas de alteración del orden público con peligro para las personas y para los bienes

y cuenta ya con una abundantísima jurisprudencia del tribunal constitucional determinando su contenido y límites su alcance y contenido

abundante jurisprudencia de los tribunales de los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso administrativo

sobre actos concretos de las autoridades gubernativas autorizando denegando

creo que no miento ni exagero cuando hago esta afirmación es enormemente garantista con respecto al ejercicio de estos derechos

al establecimiento de restricciones o limitaciones a su ejercicio libre por parte de la ciudadanía hay que recordar por ejemplo que la ley orgánica que desarrolla el derecho de reunión tiene un precepto el artículo tercero que

porque ampara expresamente el derecho de reunión y manifestación frente a quienes quieren impedir perturbar

de los servicios de seguridad lógicamente que protegen en muchas ocasiones el ejercicio de ese derecho legítimo

del tribunal constitucional y de los órganos judiciales del orden jurisdiccional contencioso administrativo

en los últimos años se ha instituido la práctica por parte de ciertas organizaciones y colectivos de soslayar la obligada comunicación a la autoridad gubernativa

recabar de los juzgados centrales de instrucción de la audiencia nacional una resolución que prohíba la celebración prohíba de manera cautelar o preventiva la celebración de esas actuaciones cuando consideran

actos delictivos y particularmente actos delictivos contrarios al artículo quinientos setenta y ocho del código

el tipo delictivo o los tipos delictivos recogidos en ese artículo quinientos setenta y ocho del código penal que habla resumidamente

o humillación de las víctimas muy básicamente por tanto más allá

fijando los límites y opinando dictando resoluciones en relación con concretas actuaciones administrativas de la autoridad gubernativa poniendo límites o prohibiendo la celebración de estos actos tenemos ya también una dilatada lista de resoluciones de los juzgados centrales de instrucción de la audiencia nacional numerosos autos que vienen dictándose todos los años usted ha hecho referencia

que recogen pautas claras recogen criterios inequívocos y casi me podría atrever a afirmar que definen una suerte de línea doctrinal clara en relación al modo en el que se tiene que proceder en este tipo de situaciones

muy resumidamente porque no tenemos ocasión ni tiempo suficiente para hacer una explicación más amplia de este tema no por una parte

se niegan de manera sistemática y casi en la totalidad de los supuestos en los que han tenido

con estos asuntos se niegan a prohibir cautelarmente este tipo de actos que pueden ser concentraciones manifestaciones

argumentando que hacerlo y hacerlo además de manera preventiva en el ámbito de la jurisdicción penal sería una vulneración desproporcionada

de un derecho fundamental dicen que esa restricción desproporcionada no es lícita y por tanto no dan pie a su materialización y en segundo lugar inmediatamente después de denegar la prohibición cautelar de ese tipo de actuaciones encomiendan las fuerzas de seguridad

de las actuaciones que puedan llevarse a cabo concretamente en el desarrollo de esos actos no prohibidos de manera que si se aprecian algunos elementos delictivos se dé conocimiento de ellos a la autoridad judicial

inmediatamente de recibir una resolución de este tipo lógicamente y no solamente por eso sino porque hay una ley vasca que lo mandata a ese respecto desarrolla su labor de seguimiento control y seguimiento de estas actuaciones

aprecia si existen o no elementos delictivos para proceder de la manera que corresponda
así ha sido y así va a ser también durante esta legislatura eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

señor erkoreka agradecemos de antemano la explicación que nos ha dado pero creemos que no es suficiente del todo por un lado el diputado en el congreso aitor esteban ha asegurado en unas recientes declaraciones públicas que las afirmaciones del líder de sortu arkaitz rodríguez sobre que los presos de eta no son violadores ni pederastas

son unas manifestaciones terribles y subrayó que los miembros de la banda terrorista no eran violadores pero que sí han asesinado han secuestrado y han violentado los derechos humanos en el tiempo en que actuó la organización armada

esto lo dicen por la mañana pero por la tarde firman iniciativas que no contribuyen a la deslegitimación del terrorismo

suscribieron un acuerdo en el que no señalaban quizá por olvido que el militante de eta igor gonzález sola estaba condenado por ser militante de la banda terrorista eta por tráfico de armas y falsificación documental con las armas con las que traficaba este individuo se han cometido asesinatos de ciudadanos inocentes en algunos casos de funcionarios públicos que han dado la vida por defender la libertad de todos en el país vasco es en la única región europea

que siguen orgullosos de su pasado criminal eta ha sido derrotada por el estado de derecho pero la prevención del terrorismo futuro pasa por asentar en la sociedad una deslegitimación clara de la violencia no busca justificaciones de ningún tipo a esas violaciones de los derechos humanos

que otorga a nuestra sociedad un carácter dramático en el caso del terrorismo

ha conseguido en buena medida su objetivo de domesticación de la sociedad vasca

había un gran porcentaje de la población que atemorizada se escondía ante el riesgo de ser señalado arruinado despedido e incluso asesinado

recuerdan con terror aquellos años en los que estaba a la kale borroka varios grupos políticos aquí presentes confunden convivencia con perdón

convivencia con humillación muchos de los practicantes del terror en aquel tiempo se sientan hoy en el parlamento y es que nosotros no distinguimos entre miembros de eta con y sin delito de sangre

es irrelevante eta fue una maquinaria perfectamente organizada en la que cada uno de sus componentes tenía la misma responsabilidad tanta culpa tiene desde el punto de vista ético

el uno sin el otro es imposible no es apostar por la convivencia que un grupo de canallas y cobardes alarguen el dolor con los más de doscientos atentados sin resolver a las familias afectadas

hacer que los vascos nos callemos olvidemos aquellos días de terror en las calles sin que nadie haya sido responsable convivencia es llamar asesinos a los asesinos

fundamental en la estructura de eta convivencia es arrepentimiento colaboración con la justicia escuchar

un compromiso por el cumplimiento íntegro de las penas de los etarras convivencia sí pero ni olvidarnos ni perdonar eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora martínez primero le agradezco el hecho de que no haya puesto en cuestión

y que no haya pretendido proyectar la actuación

sustancialmente distintas a las que yo he expuesto aquí porque creo que no habría margen para ello siempre y cuando pretendiera que la ertzaintza se condujera dentro de los márgenes legales no en segundo lugar

en su réplica emite un sinfín de opiniones particulares suyas y de otras personas

de lo que el gobierno tiene previsto hacer en relación con esa problemática que plantea usted a propósito de esos actos permítame una precisión cuando habla de que el país vasco es el único país o el único territorio de toda europa en la que se producen ese tipo de situaciones

ocasión de hacer un seguimiento estricto de los autos de la audiencia nacional de los diferentes tribunales centrales de instrucción porque

en otros territorios del estado español por ejemplo cuando una persona que ha sido privada de libertad durante mucho tiempo y sale de la cárcel

un recibimiento va a expresarle su cercanía y su proximidad y el acto no se produce territorialmente en euskadi sino que se produce en los lugares en los que se sitúan

esa idea de que el territorio vasco es el único exento de ciertas prácticas no es exactamente así no se ajusta estrictamente a la realidad

unas de mi compañero aitor esteban que suscribo desde la cruz hasta el punto final no hace falta reproducirlas las suscribo enteramente comparto plenamente esas

sin necesidad de apelar a las tomas de posición de compañeros de partido con los que hemos compartido muchas responsabilidades en el congreso de los diputados ambos ocupamos

yo me voy a remitir a la toma de posición que sobre la cuestión que usted plantea ha adoptado esta cámara hace todavía un año en una enmienda transaccional que fue suscrita insisto por la inmensa mayoría de grupos parlamentarios

la enmienda transaccional y tampoco la apoyó si bien es verdad y hay que reconocer que tampoco votó radicalmente en contra no

y aquí aparece sintéticamente recogidos pero claramente recogidos muchos de los valores que

la proposición no de ley en su última formulación después de la enmienda transaccional rechaza los actos de reconocimiento con ostentación pública a los presos de eta que salgan de prisión e insta a quienes los organizan y promueven

por respeto a una memoria crítica del pasado y para evitar que se conviertan en un elemento de división y en una dificultad añadida para la construcción de una convivencia democrática creo que es una formulación bastante completa y en el punto tercero que me gustaría destacar aquí no voy a leer

se dice que el parlamento vasco hace un llamamiento a las instituciones públicas a todas los partidos políticos y los agentes sociales a redoblar los esfuerzos para promover activamente entre la ciudadanía vasca la deslegitimación del uso de la violencia como recurso para la imposición totalitaria de proyectos políticos tanto en el pasado como el presente

solemnes hechas por esta cámara con un amplio respaldo parlamentario yo las suscribo punto por punto y si le sirven para dar respuesta a la segunda cuestión que ha planteado que no tiene que ver con los planes del gobierno en relación con este tipo de actos a los que hacía referencia en su interpelación

sobre mis opiniones particulares en relación con esta cuestión están claramente reflejadas en estas resoluciones eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

conocedora supongo de la decisión de la empresa navarra trenasa filial de la guipuzcoana caf la decisión trasladada hace algunos días

de plantear un despido colectivo y dejar en la calle a ciento diez trabajadoras y trabajadores de esta empresa navarra con las consecuencias que esto tiene

de navarra el gobierno vasco hace dos años entró

uno con poco por ciento y nosotros queríamos saber

en una comunidad autónoma vecina queríamos saber si el gobierno vasco tenía conocimiento de la decisión de la dirección de caf de plantear a través de trenasa

sailburu andrea somos conocedores de que el gobierno vasco con esa participación no está en el consejo de administración

pero sabemos o leímos hace creo que dos años cuando ustedes usted además con su compañero el señor azpiazu que está sentado al lado suyo nos anunciaron la compra de las acciones de kutxabank

de cara a garantizar el arraigo de las empresas y nosotros pensamos que este es solo un ejemplo es verdad que en este caso no son trabajadores de la comunidad autónoma vasca a nosotros nos da igual porque el arraigo en este caso en navarra que para nosotros es algo más

es lo mismo nosotros creemos que esto demuestra que esa política que ustedes a veces anuncian no es tal ustedes no influyen

no influyen en las decisiones de las empresas en las que hay

las responsabilidades sobre dinero público se las van a pedir al gobierno de navarra que es el que ha puesto también bastante dinero público en trenasa pero nosotros

es otro tipo de política que tenga mayor capacidad de incidencia

en las decisiones industriales en las decisiones de las empresas porque en este caso trenasa es una de las fabricas más viables de las que tiene caf en el conjunto del estado y los trabajadores no entienden

de una deslocalización pura y dura y lo que sí les queremos pedir porque creo que podrían estar en condiciones de hacerlo porque no supone nada es una actitud más contundente pensamos que los trabajadores en estos momentos

un mayor respaldo de los gobiernos y en este caso un mayor respaldo también del gobierno vasco por tener

suele intentar tener una equidistancia en este tipo de conflictos pero creemos que es muy exquisito con las patronales con decisiones que a veces hay que decirles que no son acertadas

y en cambio pues a veces les oímos que no son igual de exquisitos con los trabajadores o con los sindicatos este gobierno no tiene ningún problema en decirle cosas nosotros no nos metemos se las dicen no tienen problemas en decir esta huelga no es adecuada esta huelga viene en mal lugar esta huelga es política o aquí hay un contubernio contra el gobierno

pues igual hay que decirles que esta decisión no es apropiada eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna tapia andrea zurea da hitza

comentaba que nuestra participación nuestra presencia en la empresa desde hace unos años desde luego yo reitero cuál era el objetivo de nuestra presencia en la empresa caf una empresa desde luego que es tractora

de primerísimo nivel y que ayuda a que muchísimos puestos de trabajo aquí en euskadi no solo directos sino indirectos también

previamente con dos transiciones muy relevantes a las que tenemos que seguir haciendo previo al covid pero también ahora muchísimo más acelerado que son la transición energética la electrificación del transporte

vía tren o vía autobús y por otra parte la digitalización y por tanto creemos

no es menos cierto que usted mismo decía que también el gobierno de navarra del que

también el gobierno de navarra participa en una filial

y con el gobierno de navarra mantenemos una estrecha relación para hacer seguimiento de qué es lo que ocurre en esta y otras empresas y desde luego recientemente hemos estado hablando y continuamos hablando

pero la vocación del gobierno vasco no es solamente atender a coyunturas determinadas que son difíciles y tenemos que tratar de la forma más adecuada posible y siempre lo décimos de la forma menos traumática posible y en la medida de lo posible con acuerdo y tratando de que el conocimiento que existe no se pierda eso

siempre y tratamos de hacer todo lo posible en ese sentido

es desde luego acompañar a las empresas y en este caso

formamos parte y continuaremos formando parte espero que durante mucho tiempo y

sino en otro tipo de actuaciones quizá un poco más estratégicas

recordará usted que el lehendakari en julio de dos mil dieciocho estuvo presente en gales firmando un acuerdo de colaboración con esa región donde precisamente

aumentando su negocio y para al mismo tiempo con esa internacionalización garantizar los puestos de trabajo y la continuidad de la planta en euskadi sabemos que en muchas ocasiones esos procesos de internacionalización

pero es cada vez más difícil y tenemos que estar presentes en todos esos lugares y la labor del gobierno en este caso es acompañar a la empresa facilitar su implantación en otros lugares

a la garantía de empleos aquí en euskadi y esta es una de las últimas actuaciones que hemos realizado pero que continuaremos en esa misma línea siempre siendo conscientes de que la transición energética y la transición digital van a marcar

egun on denoi decretamos el estado de emergencia

qué abismo qué abismo no solo entre estas palabras

su industria aeronáutica sino en la actitud entre este gobierno y el gobierno vasco

y aeronáutica en google solo nos encontraremos con dos menciones de pasada en la que la consejera aludía a la crisis de este sector qué abismo eta larria da

hombre en términos industriales generales mejor alemania quizás pero en términos aeronáuticos quizás francia sea la referencia

fíjese con los fondos europeos la cantidad de veces que han salido y la birria que nos han presentado por no hablar power point que nos mandaron el otro día

maravilloso de recuperación que tienen y que al día de hoy son unas diapositivas

pero lo que pedimos a este gobierno es que haga un plan un plan a corto plazo y un plan a medio o largo plazo a corto plazo para minimizar los impactos para que los erte y las condiciones laborales se puedan prolongar sin llegar a despidos traumáticos

y les pedimos también que estén presentes en ese runrún de fusiones que se está dando para que esas fusiones no terminen siendo absorciones de empresas vascas por empresas foráneas porque tenemos precedentes como en itp

de los centros de decisión y lo que queremos es que ustedes nos digan no porque es la crisis que ya lo sabemos sino qué van a hacer para evitar que esa crisis destruya

vasco y algunos más en el futuro y no quisiera terminar sin hacer una alusión a la responsabilidad de las empresas empresas como itp que han ganado cuatrocientos millónes de euros en los últimos años

millónes de euros en los últimos años y que habían pedido un crédito para repartirse cien millónes de euros en dividendo y que por vergüenza torera ante lo que está pasando no lo van a hacer de momento

para repartírselo crudo que tengan también capacidad de aguantar ahora en los malos momentos con ayuda pública sí pero con la responsabilidad que han adquirido ante esta sociedad que también les ha ayudado a desarrollarse

en segundo lugar se está elaborando se está trabajando en un fondo con una empresa tractora como el airbus en un fondo a nivel del estado

otras empresas privadas y también diferentes gobiernos desde luego han contactado con nosotros y nosotros vamos a participar en ese fondo que dote de liquidez a todas esas empresas pequeñas a través de prestamos participativos y que nos permitan después permanecer en su accionariado

en euskadi y desde luego vamos a trabajar en nuevas inversiones en digitalización de esas empresas y finalmente todos esos procesos de consolidación y colaboración que se puedan dar

van a tener acompañamiento de los fondos públicos del gobierno beraz bost lerro zuzen argi eta zehatz lanean ari garenak eskerrik asko

gracias señora presidenta consejero consejeras

importante porque estamos al principio de legislatura y tenemos que saber lo que pasa con los presupuestos algo nos hemos enterado con la prensa parece que se retrasa también las comparecencias de los consejeros

que preguntásemos sobre los presupuestos que es el elemento la herramienta esencial de funcionamiento del gobierno y del país y en un momento como este mucho más el presupuesto es un momento político muy importante por el hecho en sí de los presupuestos pero también por las circunstancias y en ese sentido son esenciales porque nos están anunciando planes importantes pero eso tiene que estar materializado en el instrumento jurídico político que son los presupuestos y económico no es decir además ya se ha dicho que

del gobierno pues hablaba de la concreción del proyecto presupuestario es importante establecer la previsión de ingresos fijar

que seguimos viendo por los periódicos también hemos visto por los periódicos que

con efecto presupuestario que ustedes han mantenido recientemente

sí que esperemos que nos fije algunas concreciones y hemos conocido también a través de los medios de comunicación

información sobre que los presupuestos van a sufrir un retraso un retraso del proyecto de presupuestos para dos mil veintiuno

bueno nos resultaba un poco llamativo esta situación entendiendo que el gobierno

es continuidad del anterior y que el trabajo en la confección de esos presupuestos ya debería estar desbrozado ya sabemos ya hemos oído a su señoría pues hablar del hundimiento de la economía del desempleo en dos mil veinte

el año de la recuperación por ello mismo el presupuesto es un elemento esencial y el retraso

o preocupante en relación con que un instrumento que es esencial parece que se retrasa por eso le preguntamos sobre qué planes tiene en ese sentido muchas gracias

señor barrio comparto con usted la preocupación tanto de la situación económica como la necesidad de contar para

de unos presupuestos aprobados cuanto antes

hasiko da otra fecha clave es la para la elaboración presupuestaria es el quince de octubre

ejercicio este importe junto al déficit o tasa de referencia del dos coma dos por ciento que acordamos el pasado miércoles con la administración del estado en el seno de la comisión mixta de concierto determinarán básicamente

el retraso en la aprobación por parte de los presupuestos en este país en un momento esencial en un momento esencial cuando los presupuestos

legislatura también y la situación que hemos venido demuestran que debían ser aprobados en su momento pues para tener esa finalidad de cara

es decir a mí no es un poco contradictorio además anunciar planes económicos

que nos han anunciado recientemente el lehendakari las consejeras y no tener el mecanismo

presupuestario aún no aprobado es decir no es un poco contradictoria esa forma de trabajo quiero decir

esas cuestiones no solamente esos planes sino otros instrumentos se van a aplicar y se tienen que aplicar efectivamente en el ámbito sanitario en el ámbito educativo en el ámbito industrial hemos hablado ahora de un tema importante en relación con las empresas y el apoyo

cuanto antes y se está retrasando además entendemos que se podía haber adelantado todo este trabajo siempre se suele trabajar sobre

lo que usted nos ha dicho de dos coma cinco del acuerdo eso estaba previsto también en relación con el trabajo en ese planteamiento y eso es lo que hemos echado de menos es decir las elecciones fueron el doce de julio es

todavía los consejeros y las consejeras no han comparecido en este parlamento para explicarnos sus planes de actuación y en este sentido de los presupuestos se podía haber hecho un trabajo
mucho más acertado y a tiempo muchas gracias eskerrik asko barrio jauna azpiazu jauna zurea da hitza

cambios administrativos y organizativos a la hora de elaborar el presupuesto eso es una cuestión innegable cuando el presupuesto va con toda normalidad para junio se suelen presentar ya las directrices presupuestarias

y las vamos a aprobar el martes que viene en el consejo de gobierno de todas formas

la prórroga va a ser automática y va a ser en todo caso un plazo muy breve el que este el

en la cámara a mediados de diciembre como es la intención del gobierno y lo he planteado pues ustedes ahí tendrán la posibilidad de agilizar o no agilizar eso ya

pero en todo caso el presupuesto estará aprobado creo yo para mediados de febrero que es una fecha

además le adelanto señor barrio que el presupuesto de este año veintiuno va a ser un presupuesto valiente va a ser un presupuesto valiente queremos que de verdad afronte

endeudándonos lo que sea preciso para situar a nuestro país

de la creación de empleo y de la prosperidad hace poco dimos las previsiones de crecimiento económico

que viene y ese es un marco en el que vamos a elaborar el presupuesto y creemos que efectivamente

vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para incentivar la inversión pública y seguir garantizando unos servicios de calidad y unas políticas de protección social en un momento especialmente sensible

en la comisión mixta de concierto que blinda nuestra fortaleza y la capacidad financiera y presupuestaria

usted mismo podrá comprobar que las intenciones que hoy le transmito son firmes además y desde hoy quisiera

una vez conozcan el proyecto de presupuestos con el fin de que el gobierno les pueda tener en cuenta siempre eso sí

y en las orientaciones estratégicas que el gobierno plantee eskerrik asko

egun on azpiazu jauna cuando registramos esta pregunta

la comisión mixta y por tanto cabe decir que nos congratulamos

por cierto natural y como no podría ser de otra manera de incurrir de manera autónoma en el déficit necesario sin las limitaciones anteriores

usted ha mencionado que estamos en disposición o el gobierno lo está de endeudarnos todo lo que sea previsto o todo lo que sea necesario

los datos de recaudación que se han dado las previsiones que usted ya públicamente ha mencionado que son pues francamente malas ya en agosto se anunció un descenso de un diecisiete por ciento en comparación con el año anterior y también ha mencionado desde su departamento que rondará el veinte por ciento de reducción de previsión de ingresos a final de año seamos sinceros

negociado esta reducción notable esta contracción de la economía y de los ingresos no permitirá salvo que se adopten otras medidas alternativas al endeudamiento el blindaje necesario de los servicios públicos y tampoco

que es necesaria para recuperar los recortes de la última década por ser directos le voy a formular una serie de preguntas básicamente la primera es cómo va a afrontar el gobierno vasco

mediante qué vías va a compensar su departamento esa pérdida de capacidad para sostener la necesaria inversión pública si solo va a acentuar

si va a aplicar también medidas como recientemente mencionaba públicamente utilizando en nuestra opinión un eufemismo que es la reasignación de recursos también nos gustaría saber exactamente a qué se refiere

de autogobierno en materia económica que requiere respuestas adoptadas a la realidad vasca y esto es lo que hemos conseguido esta semana de ardua negociación antes de profundizar en su respuesta sí me gustaría trasladarle que el gobierno defendió la pasada legislatura una estrategia de reducción de endeudamiento de cara a tener nuestras cuentas

en marzo pactamos en la comisión mixta de concierto una senda de déficit

a la posibilidad de revisarla en todo caso de que si se diera un cambio una situación

cosa que se ha producido como saben en julio yo mismo cerré con el ministerio de hacienda un límite de déficit del dos coma seis por ciento para el gobierno vasco lo cual supone unos

de capacidad de gasto para este año dos mil veinte y no vamos a escatimar en recurrir al endeudamiento que sea necesario para prestar los servicios públicos y cumplir con los compromisos que tenemos sin que se vean afectados por la caída de la recaudación

y si es necesario más no es momento de austeridad eskerrik asko azpiazu jauna soto jauna zurea da hitza

señor azpiazu pero bien bienvenido sea el endeudamiento bienvenido sea el final de la austeridad tal y como ha mencionado en su intervención aunque hubiese sido oportuno

hace unos cuantos años pero en cualquier caso nosotros y nosotras sí queremos poner encima de la mesa también lo que supone el hecho de que nos endeudemos sin límite

de una modificación estructural de lo que es la política fiscal en este país porque

o ya me aclarará usted si no se hace una modificación estructural de la política fiscal en este país quién va a pagar ese endeudamiento al que nos vamos a sumar

en euskadi se recauda poco y se recauda mal se recauda casi un ocho por ciento menos que la media europea la media

millónes que nos faltaban ya antes de la pandemia para equipararnos a los estándares europeos en fiscalidad pero es que además se recauda de manera injusta se recauda mediante una estructura tributaria que incide fundamentalmente en los rendimientos del trabajo y cada vez menos sobre las rentas

en el pasado mandato en relación con la política fiscal el endeudamiento al que nos vemos abocados sin modificaciones en la política tributaria en el proyecto de país que se tiene con respecto a los ingresos no es más que tirar la pelota le instamos señor azpiazu a que ponga en marcha el órgano de coordinación tributaria euskadi para impulsar los cambios ineludibles que tiene que afrontar en materia fiscal este país consideramos que es fundamental que sea paralelo la modificación estructural
en términos fiscales con el endeudamiento eskerrik asko soto jauna eskerrik asko bukatu zaizu denbora

señor soto yo creo que no es momento para subir impuestos si subiéramos ahora los impuestos tendríamos un efecto contractivo en un momento en que queremos impulsar la actividad económica sería un contrasentido

haya que proceder a la revisión de la reforma anterior y cuando empecemos a ver la luz de esta situación complicada de la pandemia y la situación económica

una reflexión sobre cuánto de esta deuda de hoy tenemos que pagar nosotros y cuánto tienen que pagar

porque creo que es el momento de impulsar la actividad a través del endeudamiento y preservar

que yo mismo defendí esta política en madrid en más de una ocasión porque creo que son momentos de expandir

a través de las políticas públicas de gasto público etcétera es verdad que las reglas se han suspendido para el veinte veintiuno y que estas se van a establecer como tasas de referencia no pero es nos va a dar una mayor flexibilidad

otro de los puntos también del acuerdo de la comisión mixta de concierto ha sido fijar el límite del año veintiuno que en el caso del gobierno vasco es el dos coma dos por ciento es decir podremos incurrir en un endeudamiento adicional de mil seiscientos millónes de euros

la suspensión de las reglas europeas en principio nos va a permitir

lo cual beneficiará a toda la sociedad vasca sí le adelanto que el gobierno recurrirá y lo he dicho antes a la deuda que sea necesaria pero seguirá gestionando con rigor y responsabilidad no sabemos

ez gehitzea ez dugu ulertzen que la figura responsable del covid que en muchas familias persona pues un trabajador o trabajadora adicional

que además de dar clases las mismas que el año pasado

y eso se ha hecho de una forma además unilateral desde el departamento de educación sin ningún tipo de diálogo con los y las trabajadoras veinticuatro horas

no es una huelga que se convocó en respuesta a esa reunión sino

que estaba convocada por meses y meses y meses de incomunicación por parte del gobierno vasco hacia los trabajadores y las trabajadoras de la

irakasle ordezkoak jartzeko zentro batean no no nos parece normal

las situaciones que se dan en los centros de la enseñanza en euskadi que un equipo directivo tenga que verse obligado a dimitir por ejemplo o

de decenas y decenas de centros públicos en euskadi tengan que movilizarse para que se les garantice un derecho básico como es

creo que tenemos que cuidar mucho más y mejor a las personas que están haciendo una apuesta por la educación pública unas personas trabajadores y trabajadoras familias estudiantes niños y niñas que están creando comunidad que están quedando comunidad en nuestros pueblos y en nuestros barrios y que están

nuestra sociedad en definitiva republicanizar la gestión educativa

antes ha salido ese tema no solo es cambiar que también

también cambiar las formas de hacer las formas de gobernanza en este caso de la gestión educativa una comunidad educativa señor

que ha hecho un esfuerzo inmenso en la época del confinamiento en verano también y que lo está haciendo ahora en el inicio del curso por eso

esan zuen mientras los colegios permanecían cerrados nosotros estábamos trabajando cómo íbamos a saber qué situación tendríamos en septiembre

el lehendakari en este momento las elecciones

el lehendakari cuando él quiso el gobierno se ha conformado cuando la señora idoia mendia y el señor

han querido el curso el inicio de curso estaba ya prefijado cómo

en septiembre además haciendo ver que en los centros no se estaba trabajando

eskola publiko bateko zuzendariak idatzi zuena dice el señor urkullu que mientras en verano han estado

han estado trabajando el centro educativo que represento ha estado abierto todo el verano salvo la última semana de agosto lo que sí ha estado cerrado ha sido la delegación de educación en bizkaia por ejemplo hemos estado todo el mes de julio y agosto intentando contactar planificación como con el personal de secundaria ha sido sencillamente imposible no cogían el teléfono tenían los teléfonos descolgados no ha habido teléfonos

llegó el catorce de agosto sacaron vacantes para cubrir a lo largo del año en nuestro caso sacaron dos plazas más estuvimos todo el verano intentando subsanar el problema el gobierno vasco

no cogía el teléfono una vacante que salió ese catorce agosto que se ha cubierto la semana pasada última semana de septiembre sacaron un protocolo anticovid el día veintiocho de agosto la actualización cuando los centros ya tenían diseñados nuestros planes

pero no contratan a personal adicional eso sí el día de la huelga la señora mendia decretó el cien por ciento de los servicios mínimos para la

plan bat adostera sindikatuekin eta eragileekin toca colaborar y toca acordar y lo vuelvo a decir somos especialmente críticos con cómo se está gestionando este inicio de curso

y discrepamos profundamente del modelo educativo que tienen ustedes pero estamos dispuestos a colaborar y a hacer propuestas como lo hemos hecho hasta ahora por el bien de

para el futuro porue el futuro pero diría yo que también el presente pertenece a la gente que se está educando en este momento por tanto

y le respondo bastante mejor

con aspectos a mejorar sin duda pero el curso avanza con firmeza los centros son espacios seguros y vamos a trabajar junto con la comunidad educativa para que siga siendo así interpelazioan informazio faltaz

entzun eta gogoeta partekatu bat sustatu en estos últimos días me he podido reunir con las direcciones de todos los centros públicos les he podido trasladar

por todo el trabajo que están realizando en esas reuniones les he podido explicar mi visión

y también sobre este inicio de curso todos tanto yo como los directores y directoras han podido hemos podido dar

he atendido las preocupaciones propuestas y las críticas de muchas direcciones ya se han resuelto algunos problemas o se han encaminado hacia una nueva solución

los estamos estudiando para poder darle una respuesta adecuada y también me he comprometido con ellos a que durante este curso hacer otros dos encuentros más para evaluar los compromisos adquiridos y para poder planificar el próximo curso también

allá por mayo porque todavía tampoco vamos a saber cómo evoluciona la pandemia pero lo que sí sabemos es que la enseñanza presencial la educación presencial

los miembros de la comunidad educativa entendemos que tenemos que hacer y este es el camino hablar escuchar e impulsar una reflexión compartida bukatzeko

lo hemos logrado entre todos y todas

profesorado alumnado y administración y los datos así lo avalan el pasado viernes contábamos con doscientos ochenta aulas clausuradas lo que suponía el uno coma cincuenta y nueve por ciento del total de las aulas que tenemos en euskadi

como saben todos ustedes son diecisiete mil quinientos cincuenta y cuatro bueno pues según los datos recogidos hoy

hasta las ciento cincuenta y seis que suponen el cero coma ochenta y nueve por ciento es decir con respecto al número de centros afectados hemos pasado de ciento ochenta y ocho centros a ciento catorce centros geletako errefortzuaren inguruan datuak

lo voy a resumir en relación a los refuerzos que se están destinando a los centros escolares en estos momentos estamos tramitando la contratación de más de quinientos profesores y profesoras cada centro

y para lo que le interesa todos los centros educativos estamos hablando del ámbito público van a contar

todos por otra parte en la actualidad contamos con trescientos nuevos profesores para sustituir al profesorado que por diferentes motivos vinculados al covid no pueden asistir a clase

aunque no se encuentren de baja por tanto seguirán trabajando desde casa pero mientras tanto

en los centros escolares apuntar también que en estos momentos ochocientos profesores mayores de sesenta años se han liberado en un tercio de sus horas de clase

son doscientos dos más que el curso pasado esas horas las destinan

pero a su vez se han contratado nuevos profesores para dar ese tercio de horas de clase que menciono y en relación a las sustituciones señalar que en las tres semanas que llevamos de clase el cierre de septiembre lo hemos realizado

lo que supone mil cuarenta sustituciones más que el curso pasado que supone un incremento del treinta y ocho

estamos contratando más de quinientos monitores el entorno a cien personas de limpieza y treinta más en el ámbito

gracias presidenta señorías consejeros consejeras buenos días de nuevo

en esta interpelación que formulamos al señor arriola hablamos de un tema que esencialmente depende vamos a ponerlo por delante de otra administración pero que entendemos que usted como consejero de transportes

también por el éxito de las políticas públicas de movilidad de los ciudadanos de este país y esta es una importante

que las graves deficiencias en el transporte ferroviario en el país vasco y concretamente en álava se resuelvan o sea que yo creo que es una importante responsabilidad la que

servir de correa de transmisión entendemos nosotros con otras administraciones pues para que la movilidad ferroviaria de los ciudadanos y las ciudadanas de esta tierra pues se resuelva porque está gravemente afectada

interpelación es para saber qué podemos hacer

sobre todo el gobierno vasco para restablecer servicios ferroviarios suspendidos durante la pandemia

de emergencia de alerta de emergencia sanitaria e incomprensiblemente

quien tenga la responsabilidad es incomprensible no restablecer una vez de que se ha restablecido la actividad educativa la actividad comercial la actividad empresarial

esencial como es el ferroviario y como es una interpelación y que

del consejero y con la posibilidad de que el parlamento vasco se pronuncie

iniciativas sobre la mesa pues entendemos que también usted tendrá información de primera mano

y nos podrá explicar el porqué de mantener esta grave reducción en los territorios en álava bizkaia gipuzkoa fundamentalmente en álava es donde se han

alcaldes de diferentes partidos en relación con la situación es que una vez culminada la emergencia sanitaria no hay explicación alguna para que

sin embargo esta situación que se está dando en diferentes trayectos que aún no ha retomado la oferta no se ha retomado la oferta previa al día catorce de marzo

de todo el territorio pero no solamente afecta al país vasco afecta españa han pedido la reposición de todas estas circulaciones ferroviarias y eso es lo que nosotros pretendemos eso es lo que nosotros queremos qué pasa por qué no se ha restablecido esa situación es muy interesante ver además que documentos de lo que hablan es de reforzar no solamente

las cercanías de reforzar el transporte sanitario sin ir más lejos algo tan importante como la autoridad independiente de responsabilidad fiscal la airef hablaba en julio de este mismo año de eso y decía al gobierno que

incremento de la demanda de este servicio que es además el más utilizado en españa hablaba no la institución propone la airef propone

ferroviaria los criterios de movilidad son esenciales en relación con el transporte público y en ese sentido es lo contrario de lo que hoy se está haciendo por parte de quienes tienen responsabilidad en el transporte ferroviario por eso en ese sentido yo creo que

urge recuperar a las frecuencias se están dando además dentro de lo que hay de esa reducción horarios incongruentes vuelvo a decir perjudican a estudiantes y en la zona rural alavesa esencialmente

la preocupación la indignación incluso de alcaldes

a empresas a trabajadores lo que supone cuestiones que van en contra del criterio

de los coches particulares más pernoctaciones más gastos de viajes

incluso ayuntamientos que tienen que pagar taxis para completar lo que antes hacía el ferrocarril eso entra en parte de esa nueva normalidad lamentablemente

algo podemos hacer y sobre todo yo entiendo que algo puede hacer usted desde su responsabilidad

esta interpelación recordaba antes que alcaldes alaveses de otras localidades y también de localidades limítrofes no hay que olvidar la vinculación que tiene vitoria con miranda por ejemplo incluso el núcleo

han expresado esa preocupación y sus quejas recientemente por una drástica reducción de lo que ellos llamaban drástica reducción de los transportes

dándose cuenta de que eso afectaba a la vida normal a la habitual pero también a la

de planificación territorial vivienda y transportes en relación con las actuaciones del ministerio de transportes movilidad y agenda urbana para recuperar reorganizar y potenciar las líneas de conexión dentro del territorio de álava de los territorios de la comunidad autónoma y de conexión desde luego nuestra de nuestras ciudades y de nuestros pueblos con el resto del territorio español eliminadas en este estado de alarma también

gracias señora presidenta señor barrio como usted sabe y ha dicho en su intervención el departamento de transportes no es titular

madrid irún ni interviene en su explotación comercial que corresponde en exclusiva a renfe por lo tanto carecemos de los

en problema que plantea en su intervención pero esto no significa que nuestro departamento se desentienda del problema que está suponiendo para muchas personas

de varias frecuencias del servicio regional y del de media distancia

una suspensión que está afectando sobre todo a personas usuarias de diversas localidades alavesas como agurain

o nanclares de oca así como de miranda de ebro o alsasua

o de trabajo por el contrario este problema nos está ocupando desde el primer minuto apenas procedimos al nombramiento de los responsables del área de transporte la pasada semana nos pusimos

para intentar dar una salida en coordinación con el resto de instituciones alavesas concernidas y con la propia renfe

como institución aglutinante de los intereses del territorio histórico y con competencias

y puedo decirle también que esta fue una de las cuestiones que trasladé al ministro de transportes movilidad y agenda urbana josé luis ábalos en la reunión que este pasado lunes mantuve con él

en la sede del ministerio a raíz de esta reunión

pude hablar el miércoles por teléfono con el presidente de renfe

sobre este asunto y puedo decirle que ayer mismo

dentro de diez días renfe va a recuperar algunos de los servicios regionales suspendidos en marzo

en cualquier caso se me ha comunicado que

se volverá a poner en servicio el tren dieciséis mil doscientos siete que sale

y llega a la estación de vitoria gasteiz a las siete cuarenta y seis

que venía siendo utilizado por unas trescientos cinco personas en promedio semanal la gran mayoría

era una de las más problemáticas por las dificultades para darle una alternativa por carretera el otro servicio que renfe va a recuperar

que hace el trayecto inverso vitoria miranda con salida a las catorce treinta horas de la capital alavesa y llegada a su destino a las catorce cincuenta y siete frecuentaban un promedio semanal

personas desde la compañía ferroviaria también se me ha trasladado que su primera intención era reponer ambos trenes el día cinco

pero que no ha sido posible como consecuencia a razones técnicas

al corredor madrid país vasco cubierto por trenes alvia

se me ha comunicado que a partir del día nueve se repondrán dos circulaciones

san sebastián que sale a las diecisiete cuarenta horas de chamartín y los domingos

diecisiete horas de la estación de abando sin embargo por el momento

irún vitoria gasteiz utilizado por las localidades de la llanada alavesa y de la zona de altsasu que salía a las cinco cincuenta y dos horas de la ciudad fronteriza

a vitoria a las siete cincuenta y ocho ese tren también hace funciones de cercanías en gipuzkoa

oñati creo que la recuperación de estos servicios que le he comentado es un avance aunque ciertamente todavía no se alcance la oferta ferroviaria que había disponible en álava y

antes de la llegada de la pandemia renfe asegura que tiene voluntad de ir recuperando

y especialmente la demanda de los viajeros tanto en el servicio regional como el de media distancia en consecuencia mientras no se normalice la situación

ayuntamientos y gobierno vasco vamos a tener que trabajar coordinadamente para paliar este problema en primer lugar identificando con precisión el número de personas afectadas y que carecen de alternativa de transporte público para ir a estudiar

o para hacer gestiones esenciales y en segundo lugar analizando

el ferrocarril de forma temporal en este sentido puedo también indicarles que

lo marco ha concertado ya una reunión para la próxima semana foral de infraestructuras viarias y movilidad de álava en la que se va a abordar entre otras cuestiones esta que nos ocupa hoy aquí bien a alargarme más en este primer turno esto es señor barrio lo que en estos momentos responder sobre el problema que plantea en su interpelación espero que con el esfuerzo y la voluntad de todas las partes implicadas especialmente

seamos capaces de dar una respuesta satisfactoria a las personas que han visto limitada su capacidad de transporte por la reducción de los servicios de renfe el compromiso

gracias presidenta agradezco al señor arriola su respuesta

esta interpelación está clara la preocupación las noticias que nos ha trasladado son a medias

son satisfactorias porque lo normal es recuperar los servicios porque

se necesita en relación con el tráfico de las personas con la movilidad con las alternativas al transporte particular a los coches particulares

desde renfe o desde el ministerio hay una actitud un tanto cicatera

me refería antes a la indignación de los alcaldes de las zonas muy preocupados precisamente

dicho usted el próximo trece de octubre algunas líneas pero no se repone al completo

un servicio esencial de transporte que tenía que haberse recuperado en la totalidad nos llama mucho la atención

en esa reducción que supongo que llevará consigo reducción de personas reducción de personal de contrataciones lo de siempre en relación con estas cuestiones que vuelvo a decir dentro de lo que es un servicio esencial y además de todas las administraciones aquellas

con el medio ambiente de repente lo que están fomentando es con estas reducciones

más tráfico más utilización del coche particular en vez del transporte público

algo tan importante dentro de lo que es el análisis de las políticas públicas como la autoridad independiente de responsabilidad fiscal la airef con sus informes

cuando hablaba de eso una inversión insuficiente en cercanías pese al fuerte incremento de la demanda de este servicio que es además el más utilizado de españa eso decía en ese sentido es decir y la institución

para conseguir una provisión eficiente de las infraestructuras capaces de satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos con un gasto racional de los recursos bueno lo contrario en relación con esta disminución podemos decir que algo se ha anunciado

también contactando con los responsables los ediles los alcaldes

en qué medida se va recuperando pero es que urge recuperar las frecuencias esta paralización también coincide con la paralización de las obras

y los horarios además han sido los peores de todos en relación con algunas necesidades de población

de álava por trabajo o por estudios a otras localidades a madrid es decir esto está suponiendo un deterioro y abandono también de la normalidad ferroviaria es decir hemos echado de menos usted nos ha hablado ahora de algunas cuestiones pero hemos echado de menos también o

con nuestra población además es desconocer en este sentido esta reducción que se

rural favorece la despoblación si desaparecen

estas noticias no están bien y renfe responde en algún caso que hay menos demanda pero la pescadilla que se muerde la cola no que no tengan la tentación de mantener estos recortes es decir

trayectos y todas esas conexiones del campo de la ciudad y otros territorios fuera del país vasco y en ese sentido pues lo que se al revés de incentivar

privado además al gasto mayor para algunos ayuntamientos de tener que contratar

a las personas o sea que entendemos y exigiremos a través de una moción más esfuerzos le agradecemos a usted su esfuerzo pero en cualquier caso

seguir exigiendo al máximo nivel al gobierno de españa y a

señor barrio es evidente que estamos viviendo una situación de excepcionalidad sin precedentes

no se ha librado del impacto de las restricciones de actividades y movimientos

de hecho ha sido uno de los más afectados sobre todo el transporte aéreo y por ferrocarril y en menor medida el regular por carretera

el retorno del transporte ferroviario que por su naturaleza es mucho más mucho menos elástico que el de carretera está siendo mucho más lento

el hecho de que la utilización de la línea de renfe en álava y en el conjunto de euskadi el transporte ferroviario de pasajeros no es precisamente muy elevada

utilizaron los servicios de trenes regionales de renfe a su paso por álava esto supone una media

de cuatrocientos sesenta y siete personas se trata además de un pasaje muy concentrado en los horarios de primera hora de la mañana y de media tarde

pero no puede obviarse que la prestación de un servicio público no deben influir únicamente

consideraciones sociales y por lo que he percibido

que la suspensión de servicios ferroviarios supone para las personas de las localidades citadas que los venían utilizando para acudir

se han hecho eco como usted decía las personas directamente afectadas pero también los alcaldes de las localidades

de renfe a la hora de responder a su interpelación hubiera podido decirle

se ciñen a las líneas concretas en las que tiene la gestión y que en álava

fundamentalmente se refiere al tranvía de vitoria gasteiz impulsado y gestionado por euskotren un servicio

ha recuperado todas las frecuencias que tenía antes del inicio de la pandemia

y que sigue en expansión porque tras la ampliación

febrero está ya en ejecución su llegada al barrio de salburua con una prolongación de dos coma cinco kilómetros podría haberme quedado

ya ha visto que nos hemos implicado porque el problema de esas personas muchas de ellas ciudadanos y ciudadanas de nuestra comunidad

al gobierno vasco de hecho el plan director de transporte sostenible dos mil treinta de euskadi tiene como uno de sus objetivos

desarrollar un sistema de transporte público integrado esto es que los distintos modos de transporte público

a las necesidades de la población como vector de desarrollo y crecimiento apostando al mismo tiempo por la sostenibilidad económica social y ambiental y en ese modelo integrado el transporte ferroviario tiene un papel fundamental

en cumplimiento de los principios generales que deben de regir las actuaciones de las administraciones públicas

a la cooperación colaboración y coordinación entre ellas nuestro departamento va a seguir fomentando las acciones que sean convenientes y necesarias

ferroviaria que dé una respuesta adecuada a las necesidades del territorio histórico de álava

le he manifestado mi voluntad de trabajar con el resto de las instituciones concernidas y en el marco de las competencias respectivas para conseguir que se repongan las frecuencias del servicio de renfe suspendidas o en su caso para buscar alternativas que compensen

las consecuencias de esa carencia de todas formas

que las interpelaciones son para hacer mociones no son como consecuencia de sino para ello

pues estaremos cuando presente la moción en este pleno y supongo que

gracias presidenta señor fernandez de betoño se depuran responsabilidades cuando se considera

y entiendo que este no es el caso eskerrik asko arriola jauna

no se conoce obra de ingeniería o de edificación de gran complejidad que no haya tenido alguna incidencia en su ejecución y el proyecto de la variante ferroviaria de donostia san sebastián compleja y de gran envergadura con el fin de minimizar el impacto del recorrido en un entorno densamente urbano únicamente

esto supone una excavación de un total de seis coma nueve kilómetros entre el túnel de línea los accesos a las estaciones rampas de pozos de ventilación y ascensores

el noventa por ciento de este proyecto y los problemas localizados están en dos puntos de su tramo miraconcha easo en un sector de apenas cuatrocientos metros uno de ellos se ubica en el subsuelo de la plaza easo

permeable que requiere consolidar el terreno que está sobre el futuro túnel y el otro punto se sitúa en la excavación

discontinuidades y una roca que deja al descubierto una calidad de origen

origen a su vez de filtraciones en el túnel con arrastre de arena

a un pilar del edificio de la calle zubieta hacer frente a estos imprevistos supone

no recogidas en el proyecto con un sobrecosto importante y consecuentemente en aplicación de la ley de contratos

en la resolución del contrato de este tramo y en sacar a concurso un proyecto reformado

garantizando en el ínterin la continuidad de los trabajos de superficie y la seguridad de la obra subterránea le he dicho que se depuran responsabilidades cuando se considera que han existido diligencias e imprevisiones y que este no era el caso a mi entender

en las sucesivas fases del proyecto de la variante ferroviaria se ha trabajado con la información de ciento cinco sondeos y cuarenta y uno perfiles de geofísica de ellos treinta y cinco sondeos y dieciséis perfiles el treinta y tres por ciento del total corresponden a la zona que queda por excavar donde está parada la obra

y supongo que sabe que hay detalles que se escapan a los cálculos más escrupulosos

en un terreno abierto que en el subsuelo de una ciudad densamente

parece que usted está más preocupado por buscar supuestos culpables que por buscar soluciones nuestro departamento

están por lo segundo por concluir este importante proyecto cuanto antes

y con las mínimas molestias a la ciudadanía de donostia san sebastián a propósito le recuerdo que en dos mil quince cuando su grupo estaba al frente de la diputación foral de guipúzcoa paró la obra y rescindió el contrato del tramo antzuola bergara

por problemas geológicos y también por cuantiosos sobrecostes

consejos vendo que para mí no tengo eskerrik asko arriola jauna gai zerrendako

para los teléfonos móviles diseñada conjuntamente la secretaria

es una herramienta útil para la detección del covid porque permite mostrar el nivel de exposición al virus y en ese sentido informar del riesgo de contagio y también

estar de rastreo por lo tanto se muestra como una herramienta eficaz

los ciudadanos vascos pero la sorpresa para todos nosotros es que esta herramienta a su implantación en otras comunidades autónomas ha llegado con retraso y parece ser según han dicho diversos portavoces autorizados del departamento que usted dirige que ha sido debido a problemas técnicos e idiomáticos

catorce comunidades autónomas que debieron considerarla una cuestión prioritaria

ciudadanos antes que nosotros incluso comunidades autónomas con dos idiomas oficiales como puede ser galicia primero se puso en funcionamiento en castilla y león canarias murcia cantabria madrid andalucía aragón extremadura

cuatro de septiembre en galicia la operatividad en todo el estado estaba prevista para el quince de septiembre y por esas fechas ya conocimos que en euskadi pues no podía ser debido a esas complicaciones idiomáticas y

ciudadanos popular que nos haga una valoración parece ser que está operativa desde el veintiséis de septiembre pero tampoco tenemos una confirmación fehaciente sobre esta cuestión y nos gustaría que valorara tanto el retraso como que nos informe realmente si está en aplicación esta

la puesta en marcha en servicio de la aplicación radar covid pensada para conocer si un usuario o usuaria ha estado en contacto con un covid positivo

un ritmo irregular en las distintas comunidades no ha sido tan homogéneo como se ha descrito algunas anunciaron la integración de la aplicación a finales de agosto y hay comunidades en las que aún

la aplicación radar covid está plenamente operativa desde el pasado veintidós de septiembre la razón por la que se ha esperado hasta ese momento precisamente para integrar la aplicación con osakidetza ha sido y exclusivamente técnica ya que en todo momento se ha buscado garantizar la seguridad de las y de los usuarios a día de hoy

los circuitos de atención en caso de que una persona usuaria

que le indique que ha podido estar en contacto con un caso positivo eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea garrido andrea zurea da hitza

señora consejera bueno si es así y tenemos que creer

pues nos felicitamos sí que es cierto que parece ser que respecto a las previsiones iniciales del quince de septiembre pues se ha instalado

está dando algún problema y me gustaría saber si usted tiene confirmación en ese sentido de que pueda estar tardando problemas y si es así si están solucionándose o no porque de lo que se trata es al final de que esta aplicación

para la detección del virus yo no sé si son razones técnicas o no

me ciño a lo que escuchamos en su momento o leímos en su momento y

a mí como ciudadana vasca pues me hubiera gustado que hubiera estado a disposición

que el tener una dificultad añadida a la hora de tener que traducir esta aplicación

previsto con la suficiente antelación para que esta aplicación hubiera estado en fecha y en hora dispuesta

otros ciudadanos vascos entiendo las dificultades de esta aplicación pero me imagino que esas razones de seguridad a las que usted ha señalado también las han podido tener otras comunidades autónomas que parece ser que esta vez

estamos de acuerdo en que toda herramienta que ayuda a las tareas de rastreo y seguimiento de casos es bienvenida estas y otras que pueda haber pero también cabe recordar que no es la primera vez que en euskadi se recurre a una herramienta de estas características porque ya

de gran utilidad en los momentos más duros de la pandemia esta aplicación

está permitiendo a día de hoy hacer un seguimiento del estado de salud de los usuarios y usuarias y resolver sus dudas pero en cualquier caso respecto a

decir que depende ahora de la voluntad ciudadana no debemos olvidar que descargarse esta aplicación como lo fue la anterior

del número de descargas de radar covid porque es un dato que gestiona ministerio como lo hizo con las características técnicas y definición técnica de la herramienta lo que sí podemos decirles es que los códigos enviados a los positivos desde el pasado día veintidós de septiembre superan

mandados a todos los y todas las personas con resultado positivo

ha sido de veinticuatro y el número de personas confinadas por radar covid ha sido

en cualquier caso yo sí quisiera decir que ninguna de estas aplicaciones han sustituido ni sustituirán el trabajo de seguimiento y rastreo de casos y contactos un trabajo al que se dedican en exclusiva más de trescientos treinta profesionales a los que hay que sumar

salud laboral las unidades de vigilancia epidemiológica

en total cerca de seiscientos personas cifra que nos coloca dentro de los parámetros que establece la oms eskerrik asko eskerrik asko

y también en el conjunto del país con tasas por cada cien mil habitantes que nos sitúan a la cabeza de europa en incidencias de esta enfermedad en españa el necesario tránsito de personas se traduce en intercambio de virus entre quienes viven en una u otra provincia

y control para frenar los contagios y romper dicha cadena de contagios por todo ello traslado la siguiente pregunta a la señora consejera vasca

de qué manera prevé la consejería de salud controlar los contagios por covid diecinueve provocados por el tránsito de personas entre provincias

berriro ere agur bat como usted bien sabe señora martínez

salvo los confinamientos puntuales debidos a brotes importantes la movilidad de las personas entre pueblos territorios o comunidades no está restringida de manera que la estrategia es la misma

de la sociedad prevención rastreo diagnóstico y atención y sobre todo prudencia eskerrik asko eskerrik asko

el gobierno vasco tiene voluntad de coordinar pero estableciendo las medidas aquí

las prioridades de este gobierno a la hora de afrontar la crisis del coronavirus ante todo independientes la solución de todos los males el autogobierno pero no señora sagardui este asunto que tanto preocupa a tanta gente que tanto daño

no se resuelve con más autogobierno es más la mejor gestión es la centralización de competencias sanitarias y acabar con esta disputa entre comunidades autónomas y también comunidades con el gobierno central la crisis sanitaria que padecemos ha certificado el fracaso del modelo autonómico no hay duda de que este modelo no ha servido para afrontar de forma eficaz un reto de tal envergadura

de hecho este modelo se ha traducido en una disputa casi constante entre dirigentes autonómicos

a ver quién es el más guapo el más alto el más fuerte a ver quién es el más restrictivo siempre el más restrictivo jamás se disputan el honor de ser el más sensato el más coherente el más responsable y el más eficaz medidas dispares que si comparten algo

nunca son avaladas por expertos esas personas a las que se les atribuye la decisión de las que ni se ven ni se oyen habitualmente porque en realidad no están

decisiones políticas por intereses políticos y a las pruebas me remito en este gobierno todos se sobresaltaron al conocer la propuesta de acuerdo

a nadie parecía preocuparle cómo afectarían las medidas propuestas a la ciudadanía si contribuirían o no a frenar la pandemia el lehendakari urkullu y su vicelehendakari el señor erkoreka pusieron nombre a su principal preocupación

ambos defienden hacer aquí como solución a todos los males y todos vemos cómo nos va más de cuatrocientos nuevos contagios cada día en muchos lugares

un fracaso solo atribuible a este gobierno vasco aunque el señor

aludiendo al concepto de responsabilidad y huyendo de la más mínima autocrítica pero las cosas no están bien no lo está ni en el país vasco ni navarra la rioja burgos ni madrid

los lugares en los que se trabaja hay un número importante de vascos lugares donde residen también muchas de las personas que trabajan aquí por lo cual hay un gran movimiento esta crisis exige rigor científico mucha sensatez esa que se echa en falta en su gobierno y en el de los socios

tanto que en la calle las personas empiezan a temerle más a ustedes que al propio virus eskerrik asko martínez andrea sagardui

señora martínez el gobierno vasco tiene estrategia

dentro del plan bizi berri es aspirar a desarrollar una nueva normalidad en la que no haya restricciones de movimiento se puedan desarrollar actividades y educativas

y los contactos estrechos sean aislados es decir convivir con el virus de la mejor manera

el objetivo último es que nuestro sistema sanitario atienda sin dificultades el número de casos que se produzcan y durante los próximos meses

manera posible en este sentido euskadi detecta con éxito una gran proporción de casos

que se mantiene por debajo del cinco por ciento estos últimos días así mismo el número de pcr realizados unos cinco mil al día contribuye a detectar

gracias a un importante esfuerzo económico del gobierno y esfuerzo personal de miles de profesionales del sistema sanitario y esos son datos

la atención primaria atiende y diagnostica rápidamente los casos con sintomatología compatible con covid

sin demora la capacidad de gestión de nuestras competencias y recursos propios en materia sanitaria desde la cercanía y el conocimiento de nuestra realidad y junto con el comportamiento de la sociedad vasca es lo que están permitiendo mantener una evolución estable a lo largo de las últimas semanas pero no olvidamos que el covid entre nosotros y ha demostrado que no conoce fronteras no debemos poner el foco del riesgo fuera por ello nosotros siempre hemos apostado por nuestra capacidad de gestión pero de manera coordinada y solidaria entre territorios y comunidades y creo que así quedó demostrado en la reunión interinstitucional del pasado miércoles eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta miembros de la mesa señorías miembros del gobierno vasco quedan por aquí ya a estas horas

felicitarla por su nombramiento como consejera de igualdad justicia y políticas sociales

por su nombramiento que además acumula otra serie de responsabilidades que ya

la administración local y en la administración autonómica en segundo lugar curiosidad mía casi personal que es un poco mi sorpresa por la inclusión del área de justicia en la consejería de igualdad y de políticas sociales hombre es verdad que es una competencia del lehendakari el hacer la distribución de los departamentos y de la asignación de las distintas áreas y tareas en el gobierno no lo que pasa que hombre yo creo que la lógica

yo qué sé una concepción de la administración que buscara la máxima eficiencia la máxima excelencia pues a lo mejor habría aconsejado no sé por poner una idea

consejería de gobernanza pública y de autogobierno digo simplemente

pero me ha sorprendido el detalle de que el área de justicia

en el área de a lo mejor a usted también le sorprendió no lo sé luego ya

pero en fin esa es la distribución que hay y con esa es con la que todos tenemos

de la situación de los juzgados en euskadi una administración de justicia eficaz y eficiente que resuelva los litigios de los ciudadanos

la clave de bóveda del sistema constitucional y del estado de derecho la administración de justicia tiene distintos integrantes y componentes como todos saben unos son los jueces magistrados y fiscales letrados al servicio de la administración de justicia que son los antiguos

y luego están también los oficiales los agentes y demás en todo caso la competencia para la provisión de medios materiales y personales para la administración de justicia forma parte de las competencias que tiene asignada la comunidad autónoma y forma parte también de las competencias por tanto y de las obligaciones del gobierno y del gobierno vasco

los sucesivos gobiernos de nuestra comunidad llevan destinadas cantidades como usted sabe muy importantes lo que se ha ido llamando los procesos de modernización de la administración de justicia como sin duda usted pues conoce que además es una persona que lleva tiempo en la administración pública y en altos cargos

en irekia los últimos datos que hay publicados creo que son de solo dos mil dieciocho y según esos datos el presupuesto

eso era en dos mil dieciocho al menos descontando los

también altos cargos etcétera descontando otra serie de partidas

entiendo que hacen un buen servicio de las partidas que hay

pues unos treinta millónes de euros así a la alza la verdad es que es una cifra muy aproximada porque ciertamente hay que

pero bueno es un dinero razonable que se viene gastando una cantidad importante

desde hace ya bastante tiempo por tanto usted tendrá mejores datos pero en fin

que disponemos de un área consolidada ya en el gobierno que es

que va cambiando parece de unas consejerías a otras a veces

para asegurar que los magistrados los jueces fiscales y letrados de los dos lados letrados al servicio de la administración y también los letrados que se encargan de

puedan garantizar ese acceso a la justicia para todos para los ciudadanos y las empresas esa es la situación

cuál es la situación hoy en euskadi mire consejera yo por lo que me dicen vienen a verme veo leo también y casi he vivido en estos momentos lo cierto es que los juzgados viven una situación muy delicada

y que también no son capaces de ponerse al día de muchos asuntos que hay acumulados en estos últimos meses según

en la carga y demás hay muchos asuntos por tanto que están paralizados o los trámites están en el limbo

de asuntos que son tremendamente importantes de tipo mercantil civil hablo de asuntos también que tienen que ver con el tema penal

depende de que los juzgados sean capaces de liberar y de dar solución a la carga que tienen en estos momentos por qué estamos en esta situación cuál es la razón de que nos encontremos en esta situación hay dos razones principales

la primera evidentemente no se le puede echar a usted la culpa el covid la pandemia

pero hombre sí que es verdad que su departamento tendrá y tiene la responsabilidad de la gestión postcovid el segundo tema

hay una responsabilidad en el sentido de que tienen que dar explicaciones del funcionamiento de los servicios públicos es la forma en la que se gestiona la competencia en justicia y eso es en un como digo en un departamento en un área en este caso que ya está consolidada en un gobierno

no es un problema solo de esta comunidad autónoma como usted seguramente ya sabe y sabrá y le dirán también asesores en esta área señora artolazabal este tipo de situaciones hay en muchas comunidades autónomas

lo cierto es que la falta de digitalización y la falta el retraso diría yo y la falta de interconexión que esto es muy importante la interconexión entre los sistemas de gestión procesal causa sobrecostes importantes en la administración dificulta el trabajo de todo el personal

y afecta a ciudadanos y empresas y esto es algo que nos preocupa especialmente y que nos debe preocupar en euskadi los letrados y personal de justicia tienen que convivir con

que es el sistema autónomo que durante mucho tiempo y con recursos muy importantes muy importantes insisto

además de los problemas de acceso que estas aplicaciones suelen plantear cualquiera

sabe la dificultad de que los sistemas muchas veces demos con la tecla para que te validen el certificado digital el certificado digital que por cierto tenemos uno propio se podía usar el dni pero también tenemos uno propio que es izenpe estupendo hay otro certificado digital pero que evidentemente eso también hace que tengamos que establecer protocolos de interconexión

que globalmente en este país en españa se haya pagado hasta diez veces por el mismo servicio aquí también lo hemos hecho es verdad que euskadi empezó un poquito antes de lo que empezó el gobierno central lo que pasa es que hombre yo creo que ha llegado la hora de que las administraciones también se entiendan entre sí sobre todo se llegue a un punto que esto no dificulte lo que es lo fundamental la competencia no es

desde la bancada que suele apoyar a su gobierno tradicionalmente

de la forma más eficiente más eficaz y por cierto con criterios de excelencia

a esta situación nada boyante en la que se suele encontrar la administración de justicia porque esto venía de antes del covid se une un riesgo más que cierto como usted sabe señora consejera le puedo decir su compañera de escaño

existan situaciones de si no confinamiento sí es posible que haya situaciones en el futuro

y hombre esto hace que tengamos que estar preparados por eso señora consejera la interpelo hoy con toda sinceridad además espero que tengamos éxito en la gestión de este tema y le planteo una pregunta que ya conoce este parlamentario le adelanta a usted la interpelación y es el siguiente

y qué medidas piensa adoptar para corregir esta situación muchas gracias eskerrik asko gordillo jauna

la bienvenida a este parlamento yo estoy segura de que en esta legislatura vamos a tener oportunidad de debatir y de intercambiar puntos de vista y creo que además espero también llegar con usted

en cuanto a lo que es la estructura del departamento es una potestad que tiene el lehendakari y como bien usted ha dicho depende también de los objetivos que el gobierno tenga y creemos sinceramente

justicia y políticas sociales con los objetivos que este gobierno tiene para realizar y conseguir una sociedad

y transversal en el ámbito de sus políticas es la mejor estructura de la que nos podemos dotar yendo al asunto que nos ocupa su interpelación se funda en un diagnóstico que desde nuestro punto de vista no compartimos porque

no es cierta desde nuestro punto de vista sí que existen situaciones complicadas que ya venían

produciéndose desde hace tiempo y que además la situación de covid las ha podido agravar pero no existe una situación de colapso hemos compartido estas reflexiones también con el ámbito del poder judicial de los jueces abogados

usted ha puesto encima de la mesa como es la de la modernización y la digitalización del sistema judicial en euskadi

vamos haciendo cosas ya venimos haciendo cosas los diferentes gobiernos han estado preocupados en dar solución a estos temas y creo que tenemos

una justicia que sea realmente justa y que sea una justicia de verdad no como no podía ser de otra manera sí que ha habido que ir adaptándose a las situaciones

enfrentar hemos tenido que adaptar la actividad jurisdiccional de las medidas excepcionales que desde todos los ámbitos competenciales hemos tenido que ir poniendo

abordar esta situación de pandemia y las medidas marcadas venían por un objetivo común preservar la salud de las personas tanto de las que participan de la administración de justicia

y que han supuesto un gran esfuerzo de coordinación entre las administraciones y la colaboración generosa de todas las personas que conforman el mundo de la justicia durante el pasado estado de alarma existió una paralización de trámites y plazos procesales salvo los que se declararon esenciales

además y antes de la pandemia había órganos judiciales en alguna jurisdicción con

y eso se lo reconozco las consecuencias socioeconómicas de esta crisis posiblemente también hagan que se incremente la actividad de los juzgados especialmente en el orden de lo social

pero ni existe actualmente la situación que describe la interpelación ni cabría achacar las dificultades a falta de señalamiento de vistas por las tardes por tanto señor gordillo aunque la situación es compleja

en los últimos meses a pesar de las restricciones generadas por la pandemia se ha intentado con las personas y medios disponibles dar respuesta a las necesidades de funcionamiento de los órganos judiciales

la posibilidad de señalar vistas a las tardes requiere la disponibilidad de personal de auxilio en tales horarios y esta disponibilidad debe tener cobertura

y en los acuerdos reguladores de las condiciones de trabajo del personal

habilitó la posibilidad de que las administraciones establecieran jornadas de mañana y tarde con ciertas condiciones conforme a la exposición de motivos del decreto ley

de todo el personal en las mismas horas la orden del ministerio de justicia del cinco de junio de dos mil veinte para la fase tres contemplaba establecer tales jornadas

cuando no se pueda garantizar el mantenimiento de las medidas de seguridad para el desempeño de las funciones propias de los puestos de trabajo simultáneamente por todos los funcionarios que deban acudir al mismo centro es decir

más que destinada a incrementar la productividad judicial además dicha posibilidad solo se habilita hasta el veinte de septiembre en el decreto ley tres meses después el estado de alarma el viceconsejero de justicia mikel unzalu por resolución de cinco de junio de dos mil veinte ya dispuso la atención por personal de justicia de las vistas en horario vespertino

para que en los juzgados y en las oficinas en que no hubiera turno de tarde se pudieran atender las vistas señaladas

se determinaron los órganos y oficinas que tenían establecidos jornadas de tarde y con fecha veinticuatro de agosto la directora de administración de justicia dicta una resolución en la que se refiere a la celebración de vistas en horario

octubre en la que se recuerda que el límite temporal de las actuaciones excepcionales en horario

a la habilitación del decreto ley del veinte de septiembre la temporalidad limitada de la habilitación que confería este decreto ley dificultaba las posibilidades de disponer del personal para la celebración de vistas en horario vespertino

pero hasta la fecha las medidas arbitradas han permitido la recuperación gradual de la actividad judicial y la celebración de vistas en horarios de mañana y de tarde hace muy pocos días se aprobó la ley tres barra dos mil veinte de dieciocho de septiembre a medidas procesales y organizativas para hacer frente al covid diecinueve en el ámbito de la administración y esta ley sí que nos habilitado la posibilidad de establecer las jornadas de trabajo de mañana y tarde para todos los servicios y órganos jurisdiccionales hasta el próximo veinte de junio de dos mil veintiuno

y prevención de riesgos laborales por lo tanto se arbitrarán las medidas oportunas para seguir posibilitando actuaciones de horario vespertino ya sea fijando jornadas de mañana y tarde para determinados juzgados

ya sea arbitrando también mecanismos para atender actuaciones por la tarde en los juzgados o en las oficinas que no tengan tales jornadas en cualquier caso

para todos los problemas que tienen los juzgados vascos es una medida más entre las que se proponen para la plena recuperación de la actividad jurisdiccional en esta medida además

en este ámbito adjudicatura letrados de la administración y demás personal de justicia fiscalía abogacía procuradores por eso tenemos que trabajar de forma coordinada con ellos para afrontar la recuperación de la actividad jurisdiccional se han tomado hasta la fecha diversas medidas en el conjunto de las instituciones implicadas tanto por parte del gobierno estatal por el ministerio de justicia por el consejo general del poder judicial

además de las medidas relativas a la organización de las jornadas y el auxilio en las actuaciones vespertinas se han habilitado medidas como las siguientes un sistema web de cita previa para atención en los palacios de justicia para la ciudadanía y los profesionales de la justicia

a las dependencias también se han puesto en marcha sistemas remotos de conexión segura que han permitido a los letrados de la administración de justicia así como a los jueces magistrados y fiscales

también se han extremado las medidas de seguridad e higiene exigidas por las autoridades sanitarias en todos y cada uno de los espacios judiciales

se ha puesto en marcha un nuevo sistema multimedia de grabación de salas y vistas y servicios de videoconferencia y se está trabajando en el desarrollo del proyecto telelana con el objetivo de tener ese puesto de trabajo y movilidad con todas las garantías de seguridad exigibles que bueno como usted bien decía que tienen que tener

también se está trabajando en la implantación de un nuevo sistema de gestión de turnos en lo que es la atención al público para las oficinas de los registros civiles de las capitales vascas y se está avanzando en la actualización de la plataforma justicia

también se está impulsando la interoperabilidad y coincido con usted plenamente en el ámbito de que hay que mejorar todo lo que tiene que ser interoperabilidad modernización digitalización

son un número importante de iniciativas puestas en marcha para mejorar lo que es la actuación de los juzgados vascos tenemos todavía un reto por delante

seguro con su apoyo y con sus iniciativas para poder conseguir los objetivos eskerrik asko artolazabal andrea gordillo jauna zurea da hitza

gracias señora artolazabal por estas explicaciones que nos ha traído hoy a la cámara bueno en cuanto al primer tema de lo de la adscripción ya hemos debatido en esta cámara muchísimo tiempo sobre otros temas también de adscripción el tema de emakunde y tal

pero hombre usted hace trampilla con el significado de las palabras o sea una cosa es el valor justicia que usted puede vincular

la justicia social y tal y otra cosa es administración de justicia la competencia que tiene usted ahí luego puede fomentar

la justicia social a través del resto de competencias

es la distribución que hay y es con la que nosotros vamos a trabajar bien decía usted las medidas que ha planteado hombre no le gusta la palabra colapso hombre claro la palabra colapso

titular negativo de prensa que yo lo entiendo pero por las cosillas que me ha dicho al final que seguro que lo han debido preparar así un poco se ve que

ha encontrado también las páginas que he encontrado yo donde se hablaba de estos temas tampoco lo digo yo unas declaraciones de la presidenta de una de esas asociaciones de jueces y magistrados donde hablaba de esta situación

yo qué sé cómo decirlo nosotros de verdad queremos tener la mejor administración para los ciudadanos y queremos tener la administración más eficiente y creemos sinceramente que la administración de justicia

el punto fundamental sobre el que luego pivotan el resto de administraciones

es tan importante lo que pasa es que sin perjuicio de que continuemos este debate

y su equipo pues hombre lo importante de la competencia vuelvo a insistir porque va a salir en esta legislatura el tema de las competencias y que hay unas competencias que no están que están pendientes que tal

para que no existan solapamientos no existan sobrecostes y sobre todo que se dé mejor servicio al ciudadano después de todos los años que venimos ejerciendo esta competencia en euskadi qué es lo que cambia para para el ciudadano para la persona

el que la competencia la ejerza el ministerio o que la competencia la ejerza

del gobierno vasco pues hombre es el gobierno vasco el que nombra los altos cargos responsables directores en su caso viceconsejeros puedo añadir por cierto mi compañera habló el otro día también el tema de la exigencia lingüística el euskara por ejemplo en el proceso de selección de personal

todo el dinero que hemos invertido que se ha gastado dinero público que se ha invertido en la modernización de los sistemas

viene siendo un poquito complicado una quimera hablar de una cosa como son juicios telemáticos que no se han podido tener aquí como se han podido tener en otras comunidades que usted seguro que lo sabe hay otras comunidades que han podido tener juicios telemáticos nosotros aquí

pero creo que aquí no se ha podido hacer por eso yo creo que es importante

entre las medidas que ha ido citando ha dicho una que es que se han aplicado que se han creado sistemas remotos de conexión segura hombre por favor es que esto es desde hace veinte años prácticamente que usted empezó en el sector público

lo que tendría que haber de verdad es un sistema que garantice de verdad que hay efectivamente unos procesos coordinados yo no quiero decir

que permitan ejercer a los letrados a los jueces y tribunales sus competencias y sobre todo que sirvan a lo que están ahí que es servir a los ciudadanos

me decía usted que espera contar con iniciativas y apoyo por mi parte de nuestro grupo las va a tener

y todo lo que sea mejorar pero consejera yo creo que todo esto empieza por diagnosticar bien el problema no pasa nada la situación en los juzgados es mala es mala no es buena es mala que quiera usted el colapso no me gusta otra palabra bueno la situación es mala y a cualquiera que le pregunte que trabaje en los juzgados se lo va a decir porque

como usted muy bien ha dicho el señalamiento de juicios por la tarde que se ha empezado a hacer ahora con todas esas medidas que nos ha recordado pues ha aliviado un poquito pero

es verdad pero por eso yo creo que lo importante también es diagnosticar bien el problema y una vez diagnosticado a partir de ahí podemos trabajar todos juntos eskerrik asko gordillo jauna

eskerrik asko berriro mahaiburu andrea yo no hago trampillas señor

sé diferenciar perfectamente lo que es la justicia social de lo que es la justicia o la administración de justicia y lo que yo le he querido decir es que dependiendo de los objetivos que tenga un gobierno está enfocada a conseguirlos y este gobierno tiene como objetivos que euskadi sea una sociedad cada vez más justa más solidaria y más inclusiva y que con la estructura que hemos diseñado

en cuanto a lo que son las competencias decirle que el desarrollo por parte de euskadi en este caso concreto de las competencias

proporcionado mayor bienestar para los ciudadanos y ciudadanas vascas y por tanto seguiremos solicitando aquellas competencias

beneficien a todos los ciudadanos y ciudadanas que en este país vivimos somos conscientes como usted decía de la realidad compleja

pero también somos conscientes de que tenemos que seguir trabajando y avanzando y en el acuerdo de coalición

la elaboración de un plan de actuación para la reactivación de la actividad judicial porque es verdad somos conscientes

avanzar en esa situación tenemos que mejorar porque también para nosotros es muy importante la calidad de los servicios que prestamos ya lo veníamos haciendo no es algo nuevo este plan para ser efectivo requerirá de medidas realistas y de respeto a las competencias de los órganos jurisdiccionales porque para nosotros

está trabajando en el día a día y en este caso concreto de la administración de justicia tenemos agentes interlocutores diversos con los que tenemos que trabajar

este plan deberá de hacer partícipes en su elaboración a todos los estamentos concernidos y en particular a la comisión de seguimiento de las medidas covid diecinueve del tribunal superior de justicia del país vasco

y la recuperación de la actividad jurisdiccional pueden ser un estímulo para afrontar con decisión la modernización de este servicio público una oportunidad también

tiene y va a aprobar un plan estratégico de justicia este plan establecerá los parámetros para construir una justicia más ágil más eficaz y digitalizada centrada en las personas y quiero subrayarle también que hay un compromiso para aprobar un plan de justicia digital

lograr la digitalización integral de juzgados y tribunales culminar el expediente judicial electrónico desarrollar trámites digitales a través de la sede judicial electrónica e impulsar actuaciones a través de videoconferencias y ya tenemos un camino largo

me gustaría señalarle que los nombramientos de mi equipo se han publicado hoy pero que a pesar de todo el nuevo equipo de la viceconsejería ya se ha reunido y ya está trabajando y hemos mantenido encuentros con los jueces decano de los tres territorios

y vamos a seguir trabajando en equipo vamos a propiciar la interlocución de todos los estamentos implicados y en particular con los órganos rectores del tribunal superior de justicia y de la fiscalía en breve tendremos la comparecencia y en esa comparecencia pondremos encima de la mesa las líneas estratégicas confío entonces en tener la posibilidad de poder detallar

cuáles son nuestras iniciativas pero sí que tenemos un reto un reto de que la justicia en euskadi sea más justa eskerrik asko artolazabal andrea gai zerrendako

adostu gabe me gustaría dedicar mi tiempo a los hechos y las acciones y no a la política declarativa irakurri dizut duela gutxi

erreparatzea ere inportantea dela deritzot beraz hechos acciones y resultados ustedes

y catalogación y digitalización seis meses después del inicio de la pandemia cero euros

esta misma mañana el propio lehendakari ha puesto como ejemplo los dos millónes de ayudas a las pymes del sector cultural ha dado el dato de las setenta y siete solicitudes hechas pero lo que no ha dicho es que estas tampoco están resueltas y es decir cero euros a fecha de hoy también

con una hipotética resolución favorable de las setenta y siete solicitudes con la cuantía máxima establecida en las mismas

así que parece que algo no está funcionando y sobre los famosos dos millónes y medio

que las condiciones y requisitos establecidos eran erróneos y dejaba a mucha

y aun así hoy el lehendakari también lo ha puesto como ejemplo esta mañana de acciones que están llevando a cabo para hacer

y ha dado el dato de las trescientos doce resoluciones

pero lo que nuevamente no ha dicho es que de esas trescientos treinta solicitudes solo se han resuelto favorablemente cien y rechazado más de doscientos suponiendo una ejecución presupuestaria hasta la fecha de esas ayudas

sobre los dos millónes y medio previstos es decir no llega al nueve por ciento de las ayudas que ustedes han diseñado para el sector cultural como consecuencia del parón en la pandemia estos son los hechos estas son las acciones y estos son los resultados

buenos días la pandemia ha afectado notablemente la situación de los negocios relacionados con el ocio nocturno y la hostelería sabemos desde el comienzo de la pandemia que el coronavirus es por naturaleza altamente contagiosa un problema grave para que aquellos negocios en los que hay reuniones de gente desconocida entre sí por definición

hizo posible que la hostelería pudiese subsistir sin embargo la realidad de nuestro clima hace inviable pensar en las terrazas como salvavidas de la hostelería durante el otoño

parlamentarios y parlamentarias eguerdi on guztioi señora martínez ante todo quiero decirle que para mí y para este departamento la prioridad son las personas personas cuya salud queremos garantizar personas a las que vamos a ayudar a paliar los efectos de la pandemia

y le aseguro como socialista y como consejero que esta va a ser mi prioridad paso a responder la pregunta que me formula y efectivamente la hostelería es un

en alguna situación de erte ya sea de suspensión o recuperación por lo tanto la extensión de los erte y del complemento de las rentas más bajas que ha ratificado esta semana

casi la mitad de los beneficiarios de este complemento pertenecen a las competencias de mi departamento señora martínez quiero recalcar que para lograr el éxito de las medidas es

con ayuntamientos diputaciones con asociaciones de consumidores sindicatos cámaras de comercio

las asociaciones de hostelería se están enfrentando a una situación delicada y por ello hemos reforzado el sector y queremos reforzar su tejido asociativo

más de cuatrocientos mil euros para favorecer a la asesoría y asistencia de los autónomos y empresas

establecimientos clasificados en el grupo tres y cuatro vieron mermada de forma muy importante su actividad afectando a muchos locales de euskadi

que pudieran desarrollar su actividad como un establecimiento clasificado como el grupo dos

pero es un avance para el sector ir de la mano de la hostelería siempre ha sido es y será voluntad de este departamento

el programa extraordinario de ayudas covid dotado con quince millónes de euros para facilitar la resistencia y el sostenimiento del empleo siete coma cinco dedicados al turismo y a la hostelería en estos sectores hemos recibido un total de seis mil trescientos solicitudes los establecimientos clasificados en estos grupos tres y cuatro

y muchos lo han hecho paralelamente desde lanbide se establecieron otros quince millónes de ayudas de autónomos de las cuales el sesenta por ciento se dirigían

comercio y hostelería finalmente esta semana hemos presentado los bonos dirigidos a la hostelería restauración y turismo fruto de un programa pionero con el consenso de todas las instituciones

por lo tanto tenga la seguridad de que todas las personas que tienen relación con la hostelería

un interlocutor un impulsor de ayudas y de recursos que estén en consonancia con el esfuerzo que están realizando todos ellos no vamos a dejar a nadie atrás

cuanto más analizamos el problema más creo que el desastre de la pandemia en euskadi y en el resto de españa tiene como causa primera

en el servicio público creemos que es la soberbia y no lo décimos nosotros lo dice el

tuviesemos una situación tan catastrófica a nivel sanitario y económico

nuestros políticos tienen pocos incentivos para luchar por la excelencia porque saben que la lealtad de los españoles a su partido rivaliza con la lealtad a sus equipos de futbol favoritos la ideología y el partidismo tienen más peso en las urnas que en la capacitación y es que durante los meses del confinamiento sobre todo al final vimos durante el programa de aló presidente de pedro sánchez

de cogobernanza pero más allá del principio teórico de cogobernanza qué ha supuesto en la práctica la dichosa cogobernanza un absoluto de leyes y normativas en muchos casos solapadas que han vuelto absolutamente

haciendo imposible establecer una hoja de ruta fiable para continuar con el modelo de negocio en unos ayuntamientos unas medidas en otros otra aquí restricciones allá no en unos lugares confinamientos en otros no

no se han dignado ni un solo segundo a justificar con criterios científicos

por qué esa obsesión con la hostelería es profundamente injusto cerrar negocios con el argumento de la concentración de personas

entradas y salidas de colegios hospitales en donde no trabajan con tanta intensidad para evitar la propagación del virus

a los bares como los culpables de la propagación del virus y francamente no es verdad

les invito a generar unos criterios objetivos que sirvan como fundamento fiable para los hosteleros debemos ayudarles a recuperar la confianza de los clientes con subvenciones para adecuar el interior de sus locales y una vez hechas las reformas promocionar la confianza entre los ciudadanos la hostelería

mire señora martínez se lo voy a decir a usted y todos los grupos de esta cámara ya que es mi primera participación en el pleno yo soy muy respetuoso con el trabajo parlamentario lo he sido en mi trayectoria y lo pretendo seguir siendo y en especial con el trabajo del control parlamentario tanto el control por el parlamento en las iniciativas o peticiones de información que

como el control en el parlamento que es el debate con publicidad que estamos realizando hoy y aquí cada uno tiene que decidir qué papel quiere jugar yo

y los sectores del turismo y comercio en una situación excepcional es un debate constructivo y sereno

pues simplemente decirle que para un debate sereno y constructivo cuenten conmigo para otro tipo de debates o juegos
no me esperen gracias eskerrik asko hurtado jauna